son los principios inspiradores de las políticas públicas que nos planteamos en el ámbito de la política lingüística démosle visibilidad y usemos el euskera

para ello es obligación de las instituciones fijar con claridad las políticas públicas que deben fomentar el uso del euskera y concitar el esfuerzo público pero no basta con eso

la de quienes no han tenido la posibilidad de aprender euskera ha sido decisiva hasta el momento para que el número de euskaldunes progrese de forma notable y espectacular en nuestro país

euskara dakigunok eta uler dezakegunok erabili dezagun al mismo tiempo estamos trabajando para intensificar la visibilidad y el consumo de cultura la creación cultural que se produce en euskadi tiene un alto nivel de reconocimiento por su calidad y por su innovación

y con eventos e instituciones culturales con capacidad de atracción fomentar la cultura y su visibilidad es también un objetivo principal de este gobierno en las convocatorias y programas de apoyo a las artes escénicas

o a las fábricas de creación exigiremos acciones concretas orientadas a lograr una mayor participación de la audiencia así como a la atracción de nuevos públicos seguiremos planteando iniciativas desde los museos públicos desde nuestra red de bibliotecas y desde los festivales de cine música y teatro

se trata de animar a los agentes organizaciones y empresas culturales a diseñar planes que potencien la práctica del consumo y de su uso

edukitzeko la ertzaintza y el parlamento llevan ya tiempo viendo la manera de paliar esa carencia

se ha trabajado siempre con dos objetivos por una parte llegar a cubrir el máximo posible de plazas con un perfil bilingüe adecuado y por otra parte suplir las carencias

en el primer plan de euskera de la ertzaintza que usted ha mostrado hay un grupo de trabajo para mejorar estos aspectos

específicas para la unidad de seguridad de edificios ahora bien la cuestión no es simple siempre hay que conjugar los derechos laborales consolidados de agentes que ya ocupan determinadas plazas en propiedad o que llegado el caso

los plazos de preceptividad de los mismos y las necesidades reales de atención bilingüe al público y no siempre se alcanza el objetivo deseado en el tiempo deseado en cualquier caso estamos en una coyuntura esperanzadora destinamos hoy más recursos que nunca a las liberaciones

las ayudas al aprendizaje por cuenta propia son del cien por ciento el personal de la unidad de seguridad de edificios tiene prioridad para acceder

en horario laboral el presupuesto global destinado por el departamento a la euskaldunización y alfabetización este año es de un millón trescientos treinta mil euros pero sobre todo

son en este sentido ciertamente esperanzadoras prácticamente el cien por ciento de las personas que han accedido o que son candidatos

mire se lo voy a decir en castellano ya que sus actuaciones

que dirige evidencian que atienden y respetan mejor a quienes se dirigen a ustedes en castellano respétenme respétennos a los vascoparlantes errespeta gaitzazu euskaraz

el porqué de ciertas situaciones es difícil en el día a día

por eso también habría que explicar y en especial a los más jóvenes de dónde venimos y lo mucho que estamos ganando con la paz explicar por ejemplo por qué todavía no hace mucho tiempo

acudir a un euskaltegi en sus horas libres el porqué de esa situación

porque no pudieron hacerlo entonces y explicar también por qué mesedez isiltasuna incorporarse a la ertzaintza puede ser una buena opción profesional que quienes

de ser bilingües prácticamente en su totalidad ponerse en el lugar del otro ayuda a comprender mejor la realidad nuestra previsión es que en cinco años podamos conseguir que el cincuenta por ciento de la ertzaintza tenga perfil pe ele uno pero como le digo

galdera botako dut comparte el lehendakari las declaraciones de la consejera artolazabal de que seiscientos cincuenta euros son suficientes para garantizar una vida digna en euskadi

si tomamos como referencia una respuesta instantánea a una pregunta sin tener en cuenta el contexto

lo respondido por la propia consejera en la comisión parlamentaria correspondiente eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

esperaba de alguien como usted una respuesta diferente otra cosa pero veo que opta por lo fácil y se limita a defender lo indefendible y no

es una condición inherente al ser humano pero no es menos cierto que cuando no se pueden cubrir determinadas necesidades básicas o se hacen con dificultad las condiciones de vida

de lo que cualquier persona merece o a lo que tiene derecho por su sencilla condición de ser humano

cosas cotidianas de las que le pasan a cualquier ciudadana de a pie se desconocen sabe cuánto cuesta un piso en alquiler de media ochocientos euros sabe cuánto cuesta la cesta de la compra de media berrehun eta berrogeita hamar

setenta ochenta euros al mes hagamos una suma y una resta hagamos las cuentas de la abuela un alquiler comer tener agua y luz ya no hablemos de la calefacción

ahora explíquele a esas personas qué tipo de malabarismos imposibles tendrían que hacer en su día a día con seiscientos cincuenta euros cómo hacen para cubrir todos estos gastos y da igual que sume usted la prestación complementaria de vivienda siguen faltando euros para que las personas lleguen a fin de mes o para que técnicamente se les considere fuera de la pobreza de verdad

que con seiscientos cincuenta euros no es verdad que no alcance para llevar una vida digna ni para cubrir necesidades básicas a veces se le olvida o tal vez desconoce que en euskadi la vivienda los suministros y la cesta de la compra están entre los más altos del estado

y que además trabajan personas que no llegan a seiscientos cincuenta euros al mes con el empleo tampoco

que trabajan en empleos precarios y no les llega para nada y lo que es más grave el desconocimiento sobre el derecho al que tienen acceso muchas y muchas personas

en nuestra comunidad hay muchas personas que podrían y no piden la rgi uno de cada dos siguen estando en situación de pobreza según datos de la propia encuesta de pobreza y desigualdad de este gobierno

hace mucho tiempo que tener un empleo no siempre asegura poder vivir dignamente pero a ustedes esto pareciera que les da igual cuando la máxima preocupación que comunica su gobierno más en controlar un fraude que no llega al uno por ciento que en mejorar la vida de todas las personas y les da igual lo que diga caritas les da igual lo que digan las entidades sociales les da igual lo que diga el ararteko

qué decirles señor lehendakari rebajamos el nivel de vida a los cuatrocientos veintinueve euros de la prestación de paradas de larga duración

ante el camino que tenemos por delante ustedes tienen dos opciones rebajas en los derechos y en la dignidad de vida de miles de personas o soltar la mano del pp abandonar esos pasos atrás y ser valientes y buscar acuerdos con fuerzas políticas para mejorar lo que existe cuál va a elegir usted señor urkullu píldora azul o píldora morada verde

los seiscientos cincuenta euros son una ayuda para salir de una situación de necesidad

un trabajo un trabajo y un salario suficiente suficiente es lo que posibilita la garantía de una vida digna de las personas en edad laboral no los seiscientos cincuenta euros no los novecientos euros

y un salario suficiente evitar la cronificación del riesgo de la marginación y la necesidad de ayudas es el objetivo de la renta de garantía de ingresos

es parte del sistema de protección social las prestaciones se extienden a todos los ámbitos salud educación vivienda o transporte por ejemplo las personas más necesitadas pueden mantener una vida digna

de protección social global la sociedad vasca con sus instituciones y con las entidades sociales sí señora guanche lleva treinta años ayudando a las personas que más lo necesitan intentando que la brecha social sea la menor posible trabajando por la cohesión social y con todo respeto no creo acertado centrar el debate en la cuestión apuntada en la pregunta la demagogia sobre todo si se olvida y se obvian señora guanche interesadamente otras prestaciones ofrecidas a las personas en situación de necesidad reconozco que aún tenemos mucho por hacer mucho camino por recorrer para seguir reduciendo la pobreza y ese es uno de nuestros objetivos reconocidos y también

este parlamento nos solicitó una propuesta para mejorar el sistema de la renta de garantía de ingresos la consejera ha presentado el diagnóstico y ha detallado veinte medidas de mejora

y que los recursos públicos lleguen a quienes lo necesitan las situaciones de pobreza señora guanche y riesgo de pobreza me preocupan y ocupan al menos tanto como a usted

nuestra responsabilidad es garantizar un sistema que ayude a las personas que peor lo están pasando el objetivo debe ser facilitar la inserción de las personas beneficiarias

aunque sea recurrente en el ámbito político como consecuencia de respuestas o exposiciones utilizadas de manera estanca

el gobierno ha documentado ha contrastado y ha presentado veinte nuevas medidas en respuesta al mandato de un acuerdo parlamentario estamos dispuestos a consensuar

y el reconocimiento de la base que disponemos en euskadi señora guanche el objetivo es mejorar el sistema de la renta de garantía de ingresos y la protección social

afrontemos esta cuestión en serio con rigor y responsabilidad con realismo sin demagogias señora guanche porque

en barcelona o en cádiz cómo es posible vivir con cero euros señora guanche

gobierna desde hace dos años y hay muchas personas y familias que no reciben ninguna ayuda su partido ha declarado señora guanche que el sistema vasco de protección social es su modelo para españa por qué no lo aplican la pregunta es por qué es usted tan exigente en gasteiz

castelo andrea zurea da hitza eskerrik asko egun on guztioi señora san josé como bien sabe usted en el pleno de la pasada

todos compartimos en aquel pleno la filosofía de este servicio así como que es un servicio necesario en nuestra comunidad las conclusión del debate bajo mi punto de vista no pudo ser más positiva porque llegamos a un acuerdo unánime

los puntos de encuentro familiar ya que si se detectan necesidades

se realizarán por su departamento las gestiones necesarias para la puesta en marcha de nuevos servicios como usted puede observar todos los grupos parlamentarios mostramos un interés por este servicio y nos hicimos eco

los puntos de encuentro familiar prestan un servicio que tienen como fin último proteger el interés superior del menor

a los mismos para que sean garantizadas unas relaciones estables con sus progenitores fundamentalmente

en el debate se suscitaron también otras cuestiones que tienen que ver con la relación que debe de existir entre estos puntos de encuentro familiar y los juzgados a fin de que no se produzcan demoras en las comunicaciones entre un servicio y el otro

lleguen de una manera más rápida para poder ser atendidos y tenidos en cuenta a la hora de ajustar el servicio que a los niños y a las niñas se les tiene que prestar en función de la situación real que están viviendo y se está analizando por el punto de encuentro familiar el ararteko y lo mencionábamos en aquel

en el que analizaba el carácter y el fundamento de estos puntos de encuentro familiar las condiciones en las que debe de prestarse el servicio y la necesidad de una coordinación con la justicia señora consejera en realidad las conclusiones a las que llegamos el pasado día ocho de junio en este parlamento pueden considerarse y así lo dije en esta tribuna como un respaldo unánime que esta cámara daba para que departamento continúe trabajando en la línea que ha emprendido desde el inicio de esta legislatura

del servicio sobre los puntos de encuentro familiar lo que a mí me gustaría hoy es que usted concrete la visión de los puntos de encuentro familiar que tienen desde su departamento y sobre todo que nos dé cuenta concreta de los pasos que han dado desde el departamento y los que van a dar en un futuro próximo es por ello por lo que desde el grupo socialista

qué acciones tiene previsto realizar el departamento de trabajo y justicia

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi señora castelo comparto plenamente las conclusiones del debate del pasado ocho de junio en esta cámara

y que me proporcionó más elementos de análisis a sumar a la propia decisión

permítame en principio que realice una reflexión sobre los puntos de encuentro familiar por derivación judicial y es que la necesidad de que lo prestemos ese servicio desde la administración deriva de dos premisas

a mantener en las mejores condiciones las relaciones paterno filiales y cubrir esta necesidad en el caso de que al no lograrse el acuerdo entre las partes los progenitores

personalmente apuesto por la justicia restaurativa y por la mediación como sistema de resolución de conflictos

entre las partes debe intervenir el sistema judicial y por la administración debemos prestar y poner los medios al alcance para que las resoluciones judiciales puedan ponerse en práctica en cualquier caso concibo este servicio como un instrumento garantista y de carácter temporal siempre será visto como un éxito que la relación entre hijos e hijas y sus progenitores pueda realizarse al margen de este servicio de ahí la importancia que tienen los informes que elaboran los profesionales para servir de elementos de apoyo a las decisiones judiciales

a los puntos de encuentro familiar y en ellas constatamos varias de las cuestiones que sus señorías reflejaron en el debate

había hecho partícipe el ararteko en su informe del año dos mil trece quizá la más importante de las deficiencias detectadas

de algunos de los servicios pero también nos preocuparon los desplazamientos excesivos que debían realizarse en otros casos para acceder a este servicio por lo tanto la primera decisión que tomamos fue la de ampliar

nos parecían mucho más acuciantes inmediatamente nos pusimos en contacto con los ayuntamientos y mancomunidades que consideramos podían colaborar con el departamento en esta acción

fueron los puntos que podrían ofrecer mejor solución al problema puedo asegurarles señorías que sin perjuicio de las condiciones que se deriven del análisis que ustedes nos han instado a realizar la ubicación de los nuevos puntos de encuentro familiar en estos tres municipios va a contribuir a mejorar

junto con la nueva ubicación locales más amplios y mejor dotados del de bilbao

hoy contamos con un principio de acuerdo en los tres casos y espero que en breve firmemos los convenios

sobre la base de los locales de estas instituciones podamos prestar el servicio que será financiado en su totalidad por la dirección de justicia quiero recordarles que esta dirección destina alrededor

cantidad que lógicamente se verá incrementada con la puesta en marcha de los nuevos puntos de encuentro familiar tendremos cinco puntos en bizkaia bilbao portugalete que atiende también zalla barakaldo durango y gernika dos en gipuzkoa donostia y tolosa y uno en álava el de vitoria

para todos los puntos de encuentro familiar y está prevista la revisión del decreto regulador de los mismos

muchas gracias señora presidenta muy buenos días señorías señor lehendakari como ya ve que tengo buen carácter hoy voy a hablar bien del gobierno

yo le ponderaba el valor de la coordinación política

cuando se busca una sintonía que tiene como objetivo atender las prioridades de la sociedad y creo que en este caso

entre los partidos políticos que yo represento y el que sustenta a su gobierno y al que usted pertenece y entre los gobiernos también de la nación y el gobierno vasco yo creo que hay una feliz y afortunada colaboración y me parece bien participar en eso muestra es la junta de seguridad que se ha celebrado

y el secretario de estado junta de seguridad que ha sido particularmente fecunda y de la que han

para lo que es una preocupación que todos compartimos que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las sociedades modernas desde luego la principal amenaza sobre europa sobre el mundo en general que es la amenaza del terrorismo de la red yihadista ustedes expresó que esa y la ciberseguridad son una de las prioridades y los desvelos que tiene y no me extraña que a usted le preocupe

y la participación del acceso a la información la participación en el centro de inteligencia

la participación también en los sistemas de intercambio policial o la propia

decisivos que ponen fin también a etapas de incomprensión enfrentamiento o prejuicios por tanto quería poner en valor y quiero poner en valor

hoy las leía también en un medio de comunicación en la que afirma que en todo caso el cálculo de número de efectivos que tiene que tener las fuerzas de seguridad en euskadi es una competencia exclusiva

fijar cuáles son sus efectivos creo que eso viene a zanjar también una demagogia habitual en esta cámara que quiere infravalorar también las competencias que otros cuerpos

realizan aquí en defensa de nuestra seguridad y me parece que eso también pues al no caer en esa demagogia en esa búsqueda del enfrentamiento de la ruptura del conflicto pues va a redundar en el bien de todos creo que la gente en general la calle lo que quiere es que se le proteja y

como sabe que eso tiene que hacerse desde la inteligencia agradece también que se haga este esfuerzo así que ya ve qué contento estoy

leí las declaraciones de mi ex compañero y portavoz del parlamento en madrid aitor esteban en la que decía que no participaban en el pacto antiyihadista porque no le dejaban participar en la información y porque tenían problemas con la tasa de reposición desaparecidas esas razones no le parece

lo que tenga que hacer el grupo vasco en las cortes

en todo caso y alabando también su intervención en lo que es poner en valor la coordinación yo le quiero decir que mí apuesta por la coordinación política es permanente que soy y somos conscientes además en lo que es nuestro ámbito de responsabilidad de gobierno posición de minoría no solamente en esta legislatura sino desde el primer día de la anterior legislatura y además que esa disposición a la coordinación política es

la coordinación con todos los grupos parlamentarios en esta cámara y con las instituciones

parto de una consideración y es que coordinar es llevar a cabo en sintonía una acción común

defiendo por lo tanto la coordinación política institucional entre el gobierno vasco y el resto de instituciones y también con el gobierno español coordinar para mí también es la consecuencia de la voluntad de la disposición a la colaboración y siempre desde el respeto a la capacidad y competencia de cada cual

la última fase previamente creo que es obligado cumplir lo acordado la coordinación política como usted decía viene dando sus frutos y ha dado sus frutos en autogobierno es relevante para mí también el acuerdo del cupo que deberá ser aprobado en las cortes el acuerdo también en la junta de seguridad a la que usted ha hecho referencia para renovar la ertzaintza

y ahora además tenemos el reto de avanzar por otra parte en lo que a nosotros nos respecta en la ponencia de autogobierno a través del modelo acuerdo pacto y esto es también coordinación política señor alonso y yo se lo quiero plantear también entre el gobierno vasco

al servicio del país y ojala que esta voluntad fuera también en el contexto político institucional español entre lo que es la coordinación y la colaboración

clima que usted ensalza a pensar que tenemos el reto de consolidar la normalización de la convivencia de que hemos avanzado de que eta es ya una

y una buena señal sería su incorporación la del partido popular a la ponencia parlamentaria señor alonso con ausencia voluntaria política no hay coordinación política posible en todos los términos esta es la invitación que yo también le hago de la misma manera que usted me hace una invitación

debería usted tener una relación más estrecha con su grupo parlamentario en madrid no sea que le vayan a negociar los presupuestos a sus espaldas supongo que algo que tiene que ver con eso y con lo demás

muy bueno para el conjunto de los vascos eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

el pacto yihadista a nosotros lo que nos corresponde es gestionarlo aquí en la comunidad autónoma del país vasco desde lo que es la colaboración de la ertzaintza en lo que es la participación en el citco

y también en lo que pueda ser su participación en el ámbito

están abordándolo desde aquí desde nuestro ámbito competencial

con las también entidades que trabajan en esos ámbitos en lo que es nuestro ámbito de territorio de la comunidad autónoma del país vasco sumarnos al pacto antiyihadista en el estado español nosotros lo haremos desde lo que es nuestra colaboración

en toda esta materia en lo que es nuestro ámbito competencial no le quepa ninguna duda usted ha dicho cuáles han sido las preocupaciones relevantes que para mí tiene y retos que tiene la ertzaintza

terrorismo antiyihadista y la ciberseguridad lo ratifico desde lo que es nuestro ámbito competencial así lo vamos a hacer eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lo diré sin rodeos creo que es nuestra obligación hacer llegar al pueblo de cataluña y a sus legítimas instituciones todo nuestro apoyo

en la que la deriva autoritaria del estado español parece estar preparando toda su maquinaria para atropellar y pasar por encima de los derechos democráticos de cataluña

o quién sabe si otras medidas mayores empleo de la fuerza o no no sabemos a qué se refiere el gobierno español cuando dice estar dispuesto a todo

pero en todo caso ninguna de esas medidas nos causaría sorpresa el parlamento de cataluña trabaja durante estos días en la comisión de investigación que trata de aclarar qué se esconde

datos absolutamente escandalosos que en cualquier país europeo mínimamente democrático habrían supuesto la inmediata caída del gobierno de turno en españa no pasa eso

sin que nadie mueva un dedo para investigar quién graba y por qué graba en el despacho del ministro

javier de la rosa el pequeño nicolas torrenteren pelikula batere

atropello brutal hacer arrodillase a una institución el parlamento vasco nacido de la voluntad del pueblo horixe horixe parlamentu honi dagokionez

reclamar el autogobierno que ya tenemos reconocido demandar la transferencia de los instrumentos y competencias pendientes reivindicar la bilateralidad

y el futuro está abierto es posible avanzar desde el respeto al principio democrático y al principio de legalidad esta es una cuestión estructurante para la sociedad vasca y por lo tanto demanda el trabajo y la atención que le estamos prestando en la ponencia de autogobierno todos participamos en esta ponencia

a ser posible entre todos y si no entre una mayoría amplia este es desde luego nuestra aspiración horretarako ezinbestekoa da desberdinen arteko adostasun zabalena

así pues este próximo lunes mantendré sí una reunión con el presidente

hemos compartido con anterioridad la necesidad de propiciar una solución política a las demandas de naturaleza política que se plantean en un estado que debe asumir

la variante sur ferroviaria es una infraestructura que se planteó hace más de veinte años señora tapia

su objetivo era agilizar la salida de las mercancías por ferrocarriles del puerto de bilbao a través de un trazado alternativo al de la red ferroviaria actual de adif para evitar el tránsito de los convoyes por los núcleos urbanos de ezkerraldea y mehatzaldea visto desde ese punto de vista

uno porque como he dicho evita el tránsito de convoyes de mercancías por el centro de los núcleos urbanos

y por otra parte porque permite trasvasar las mercancías de la carretera al ferrocarril que debe ser una tendencia que se debe convertir en uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático en el ámbito del transporte

en dos mil quince por el ministerio de fomento adolecía por un lado de una importante falta de información a la ciudadanía y suscitó una enorme cantidad de quejas y alegaciones

el pasado mes de marzo usted en representación del gobierno vasco anunció un acuerdo con el gobierno central para retomar las obras de la citada infraestructura que se ejecutarían en dos fases por un lado la fase primero santurtzi olabeaga y por otro lado la segunda hasta basauri

de gobierno vasco ha dado el visto bueno a la firma del convenio con el gobierno de españa para la construcción de la citada fase primero cuya financiación será asumida

ahora bien antes de la firma del citado convenio desde elkarrekin podemos hemos pedido su comparecencia porque el proyecto nos suscita

que creemos que son importantes y a las cuales le quería interpelar

el proyecto presentado por el gobierno central en dos mil quince como le he dicho suscitaba un gran número de quejas y alegaciones que aún no han sido respondidas por el ministerio de fomento entonces en ese sentido no parece lógico que luego parece lógico que alguien no sé si el gobierno vasco o el propio ministerio que no retome las obras sin antes haber dado una adecuada respuesta y solución a esas demandas de la ciudadanía que no solamente las presentó la sociedad civil sino también las instituciones de la margen izquierda

que precisaría el trazado para minimizar el impacto social y ambiental de la infraestructura desde elkarrekin podemos obviamente defendemos el derecho de la ciudadanía

porque como he dicho no solamente fueron presentadas por particulares sino por asociaciones y entidades de la sociedad civil y también por gran número de administraciones locales

en los pasados meses ha tenido una reunión con los alcaldes de los municipios afectados pero de esa reunión

que no fuera respecto a la financiación del proyecto y no tanto respecto al trazado definitivo de la variante sur ni sobre los detalles del proyecto

y que también se haga lo posible por fomentar la participación vecinal y social en la búsqueda de soluciones y en ese sentido le quería preguntar obviamente si va a ser su departamento quien dé contestación a las quejas y alegaciones presentadas en su día

las medidas que sean necesarias para reducir el citado impacto social y ambiental antes de la firma del convenio porque si me centro en lo relativo al impacto social y ambiental bueno es evidente que la mayor parte de los impactos se producen en el municipio de baracaldo

diferente que es el impacto que acarrea o que inducirá la variante sur cuando entre en funcionamiento en aquellos tramos donde

pues porque según el proyecto presentado en dos mil quince por el ministerio

conllevará un incremento considerable del tráfico de mercancías estimado

desde diecinueve trenes diarios hasta setenta y dos en ambos sentidos de circulación claro este aumento de tráfico ferroviario va a ser un problema muy serio en

pero también en todo el término municipal de basauri desde el calero hasta uriarte

una vez más los privilegios de los despachos la instalación de un falso túnel

no nos parece mal esa solución si es cierta si no fuera porque

pero en este punto también vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad que no nos suelen reconocer ustedes como oposición y queremos plantearle una alternativa y otra posibilidad de solucionar la problemática que se va a plantear en esa línea cien tres a través de la utilización como alternativa

creemos que de esa manera se quitaría el tránsito de convoyes de mercancías al aire libre

que es realmente lo que la variante sur pretendía en su día hacer para la margen izquierda

si además se acompaña esa conexión con el equipamiento con un tercer hilo del túnel en la y vasca

y europeo por su interior y eso significaría y esto sí es realmente importante

y que esa conectividad nos permitiría sacar las mercancías por ambos anchos de vía por un lado hacia europa a través

a través de la red ferroviaria de adif en resumen

es de un apoyo crítico sustentado en tres pilares uno que es evidente la necesidad de evitar

pero por todos los núcleos urbanos no solo los de la margen izquierda dos

a toda costa que el impacto social y ambiental de la infraestructura sea el menor posible especialmente en el municipio de barakaldo que es donde es mayor y en tercer lugar hay que conseguir que la nueva infraestructura sea complementaria con las dos infraestructuras que se pretende tener

económica y social muchas gracias eskerrik asko

la variante sur ferroviaria tiene como objetivo desde luego mejorar la competitividad del puerto de bilbao tratando de mejorar la situación de salida de mercancías por vía ferroviaria

tratemos de pasar muchísimo de ese tráfico que tenemos en nuestras carreteras hacia el transporte ferroviario que hoy desde luego dista mucho de ser competitivo y por otra parte

cada vez más la frecuencia de esos trenes hace que las molestias que se generan para muchísimas personas sean casi inasumibles además va a ser parte de una futura conexión con la alta velocidad y por tanto permitirá conectar el puerto de bilbao en dos anchos en el ancho ibérico y en el ancho europeo

hablábamos de ejecutarla en dos fases como usted bien decía en primer lugar hacer que la línea sacáramos vamos a decir o ejecutáramos

de tal manera que la siguiente fase fuera la que

llegara desde barakaldo hasta bilbao hasta basauri y arrigorriaga

sí es cierto que barakaldo queda para una segunda fase y los tráficos de los que usted hablaba evidentemente son los tráficos máximos cuando esté ejecutada

la obra completa la segunda fase también de la obra

determinados momentos cuando esté ejecutada una primera fase y entre tanto se termina la segunda habrá que compaginar

puesto que se va a aumentar el tráfico ferroviario y en eso estoy de acuerdo con usted que tendremos que tratarlo muy bien entre tanto no se termine la segunda de las fases decíamos

tenemos que modificar como usted bien decía también el estudio informativo que ha formulado el ministerio en el año dos mil quince porque

a la gran mayoría de las alegaciones que se han presentado tanto por ciudadanos particulares como por distintas instituciones y asociaciones y lo que pretendemos y así queda recogido tanto en el protocolo como en el convenio es la redacción de un nuevo estudio informativo que recoja esas alegaciones que las conteste y las recoja y que además se abra

que permita volver a hacer alegaciones y que sea lo más transparente posible con toda la ciudadanía es un estudio informativo que elaboraremos contestaremos ejecutaremos de forma conjunta con el estado queda recogido en el protocolo por tanto no es solo que vamos a contestar a las alegaciones del estudio informativo del dos mil quince sino que recogiendo mucha parte de las alegaciones y es lo que comunicamos a los municipios cuando tuvimos esa reunión se ejecutará se pondrá en funcionamiento un nuevo estudio informativo que volverá a ponerse

y tengamos en cuenta todas esas alegaciones y algunas otras que puedan surgir

esa es la voluntad además se recogerán las afecciones ambientales como no puede ser de otra manera

que después será informado por parte del ministerio de medio ambiente sabemos además que este informe tiene naturaleza de informe preceptivo y además vinculante y que si procede o no ejecutar ambientalmente en la parte ambiental me refiero de una determinada manera el proyecto constructivo futuro las condiciones en las que se debe desarrollar

y si va a tener que actuar con medidas correctoras e incluso con medidas compensatorias bueno es la forma habitual de hacerlo pero en estos momentos

adelantando lo que puede ser ese estudio de impacto ambiental atendiendo a todas esas inquietudes que estaban presentadas por administraciones y ciudadanía en general presentadas al estudio informativo previo de tal manera que queremos como no puede ser de otro modo tampoco minimizar en lo posible las afecciones de esta infraestructura decíamos además que va a mejorar la vida de más de doscientos mil ciudadanos

en el convenio de colaboración lo conocen ustedes aparece una primera fase entre el túnel de serantes y olabeaga

aproximadamente cuatrocientos millónes de euros cuatrocientos sesenta millónes de euros en lo que se refiere a la infraestructura que va a ser la que va a ser ejecutada de acuerdo

es decir ejecutándola por parte del gobierno vasco con una encomienda de gestión que está en el convenio y a partir de ahí descontándolo del cupo además la redacción del proyecto constructivo también queda en manos del gobierno del gobierno vasco en este caso y son más de siete millónes de euros

prevemos que estaría finalizado alrededor del año dos mil veintidós y a partir de ahí además tendrá que ejecutarse la súper estructura que como en el caso de la y vasca queda en manos del estado la segunda fase barakaldo basauri que realmente es la que afecta al municipio de barakaldo como usted decía

a tramos tan largos lo único que se recoge es un estudio informativo la ejecución de un estudio informativo donde por supuesto tendremos en consideración todos esos aspectos que usted mencionaba y evidentemente también la propuesta de mejora que usted

y vamos a tratar de buscar con ese estudio informativo exactamente igual que en el de la primera fase la mejor de las obras para ciudadanos y para mercancías que cumpla

objetivos en definitiva es una infraestructura ferroviaria que consideramos estratégica para el devenir de euskadi que lleva mucho retraso que pretendemos adelantar utilizando la vía del cupo la vía del convenio y del cupo y que desde luego somos conscientes

y que además tiene que servir a un puerto que tiene que hacer un tránsito de tener la mayor parte de su circulación de mercancías por

es un hito muy importante el que se pueda dar marcha a esta infraestructura y que además quiero insistir en que va a tener los dos anchos es decir tanto el ancho europeo como el ancho ibérico y que va a permitir que tanto el tránsito de mercancías hacia europa como hacia la península quede perfectamente garantizado en unas condiciones mejores de las actuales

intentaremos atender a todas esas alegaciones de esos ciudadanos y ciudadanas que viven en ese ámbito y a los que de una forma o de otra va a afectar también el tránsito de esta infraestructura por tanto yo desde luego acepto y bueno acepto e intentaré

vamos a trabajar en ese estudio informativo de la segunda fase también que está bastante más retrasado que la primera también se lo

como siempre que abordamos una infraestructura de estas dimensiones y características eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea becerra jauna zurea da hitza

se refiere a la tramitación administrativa me ha dejado más tranquilo el hecho de que efectivamente reconozcan que

generaba muchas quejas y alegaciones y obviamente es una buena noticia saber que se va a reformular y que se va a poder por lo menos tratar de atender a esas demandas

que puedan implicar medidas correctoras o medidas compensatorias yo le pediría que fuesen un paso más allá

especialmente en el municipio de barakaldo que es el más afectado para que las medidas correctoras y compensatorias sean las menores posibles sobre todo las compensatorias usted ha dicho y creo que erróneamente que los impactos en barakaldo se producen con la fase dos

entonces me parece muy importante el estudio que se puede hacer ahora porque ahí es donde tenemos

para que se haga una idea los impactos ahora mismo según el estudio del ministerio de fomento de dos mil quince eran que el trazado pasa por ejemplo por debajo de la celda de lindane de argalario

que un viaducto va a cruzar por encima del barrio de gorostiza apenas a siete metros de altura de las casas hágase una idea de que eso es la primera grada de este salón y por un viaducto de ese tipo va a circular

y eso es un impacto muy grande porque además en el barrio de gorostiza partiría el barrio por la mitad y en el mismo polideportivo de gorostiza se planteaba una subestación eléctrica

olabeaga la infraestructura afectaba a varios caseríos considerados como patrimonio cultural que los impactos en la fase uno eran importantes bien y me alegra oír que por lo menos se va a replantear esa cuestión respecto de lo que decía usted de la fase dos la preocupación que tenemos es que una vez que se acomete la fase uno que tiene un coste muy importante porque cuatrocientos sesenta millónes es un coste muy importante

el riesgo que existe y yo creo que es un riesgo real es que la fase dos

un coste aparejado también muy grande y porque la misma complejidad de la fase uno provocará el retraso de la fase dos entonces usted dice bueno el impacto en cuanto a circulación de mercancías en el municipio de basauri en el barrio de la peña y demás

yo no coincido con usted en esa consideración porque los tráficos máximos que va albergar la infraestructura van a depender de la actividad económica del puerto entonces obviamente los setenta y tantos convoyes van a depender de que el puerto exporte más mercancías o menos mercancías no de que tengamos construida la fase uno o la fase dos entonces si no tenemos

y si no hay posibilidad por presupuestos de que la fase dos

corremos el riesgo de que haya municipios en este sentido de segunda y otros de primera porque basauri la peña van a sufrir van a seguir sufriendo el traslado de mercancías

durante muchos años entonces me alegra también que se planteen que una de las posibilidades podría ser utilizar

sin tener todos los conocimientos técnicos creo que sería una posibilidad y además creo que esa posibilidad

usted sabe que nosotros somos muy críticos con la y vasca consideramos que es una infraestructura innecesaria y es una infraestructura que además

durante su día a día entonces la única forma de hacerla social y ambientalmente rentable pues es darle un uso para el transporte de mercancías que es lo que hemos defendido desde elkarrekin podemos desde siempre desde la campaña electoral entonces le invito a que lo contemplen realmente porque

al erario público y creo que es una cuestión por lo menos a estudiar

señor becerra quizá me he explicado muy mal y efectivamente tal y como usted citaba el momento crítico no va a ser en la fase segundo va a ser terminada la fase primero mientras

muy mal efectivamente cuántos trenes van a pasar va a depender del tráfico de mercancías

que dependerá de eso pero también dependerá de los servicios que quien esté operando esos trenes de mercancías sea capaz de ofrecer considerando que haya

que todavía no hemos sacado las mercancías de su centro eso está claro en segundo lugar la declaración de impacto ambiental

determinará si procede o no en principio no vamos a decir si va a proceder y si va a decir que tiene que haber medidas compensatorias o medidas correctoras puede decirlo pero vamos a intentar como le decía que el estudio informativo recoja la mayor parte de las alegaciones de los ciudadanos y las instituciones tanto de carácter social como ambiental

evidente yo creo que en cualquier estudio de impacto ambiental nuestro objetivo es ese

recogen en el proyecto constructivo pero lo ideal es no tener que aplicarla en eso estoy absolutamente de acuerdo

me comentaba también que la fase segundo puede quedar sin ejecutar

pero bueno hay un elemento que nos lleva a decir que vamos a ejecutar y que hay voluntad de ejecutarla por las dos partes por qué

ejecución del estudio informativo que la vamos a empezar a ejecutar ya a partir del mismo momento en el que se pone en funcionamiento de estudio informativo de la fase primero y en segundo lugar el convenio que está acordado ya por las dos instituciones recoge que la administración del estado asumirá el coste de la obra de la superestructura de ambas fases

por un importe además lo cifra en ochenta y cuatro coma siete millónes de euros es decir si bien la obra civil todavía la tenemos que pasar por un estudio informativo

evidentemente siempre estos números son previsiones hasta que empezamos a ejecutarlos pero sí queda recogida la voluntad de ejecutar el segundo tramo también por tanto vamos a tratar de buscar a través de ese estudio informativo la mejor de las obras la mejor de las situaciones para las personas que viven en todo ese ámbito

y arrigorriaga y que nos permita las dos cosas por cierto buscar la mejor salida para las mercancías y buscar la mejor salida para los ciudadanos y sí quiero recordarle una cosa la y vasca siempre desde el momento en el que se planifica

ha sido considerada y planificada para que recoja tráfico mixto

y ejecutada en cuanto a sus pendientes curvaturas posibilidades de llevar tráfico de mercancías está diseñada y se está ejecutando para que sea posible luego

si algo pusimos en euskadi sobre la mesa fue que esta infraestructura sirviera para las dos acciones y obviamente en el caso de la variante sur lo que pretendemos es que

y que pueda ser en un momento conectada también con esta infraestructura que nos permita salir hacia europa y que nos permita salir tanto en ancho ibérico como en ancho internacional hacia

vamos a hacer todo lo posible porque este proceso de estudios informativos sea lo más transparente posible se haga de la mejor manera posible se recojan todas las alegaciones y los estudios de impacto ambiental y por supuesto respondamos
a los dos objetivos que tiene la infraestructura eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta señora consejera la interpelo en nombre del grupo popular sobre el proyecto de ampliación del tranvía a la zona sur de vitoria como ya le dijimos

antes de poner en marcha el plan de movilidad sostenible y espacio público de vitoria sin atender a un diagnóstico integrado previo sin tener en cuenta las infraestructuras existentes en ese momento este plan de movilidad abandona la idea del tranvía a la zona sur y propone autobuses de alta capacidad para el eje este oeste aquí en este plan se habla de ampliación del tranvía a las nuevas zonas salvo este proyecto

en el plan de movilidad sostenible y espacio público se acuerda establecer canales de participación para la implementación de la red de transporte público cosa de la que carece

participación de las asociaciones vecinales para llegar a un acuerdo sobre la red de transporte público cosa que no han participado en este proyecto en este plan se realiza un informe de la realidad se recoge la incertidumbre del modelo de movilidad dado que llega el ave y no se conocen los detalles recomienda que se traten conjuntamente la movilidad

de ampliación del tranvía y la entrada del ave esto lo decían esta semana

los vecinos demandan conexión con los polígonos industriales esta ampliación del tranvía no les soluciona esta demanda los vecinos demandan conexión con el hua las consultas de txagorritxu que tampoco les proporciona este tranvía les deja lejos y les va mucho mejor la línea ocho de autobús

la universidad el campus la inmensa mayoría de las personas que van al campus no acuden en tranvía y los que acuden lo hacen

tardarían más tiempo se eliminan doscientos plazas de aparcamiento en la zona tal vez a los funcionarios de osakidetza les podía interesar pues tampoco les aporta ningún beneficio

por lo tanto señora consejera nos encontramos ante un proyecto no avalado por ningún informe de movilidad de las personas de la zona

proyecto que no da alternativas a las necesidades de movilidad de la zona proyecto demandado por las personas que van al campus proyecto

enfadados además porque les eliminan las plazas de aparcamiento señora consejera por qué el gobierno vasco se empeña en impulsar este proyecto de ampliación en el tranvía a la zona sur de vitoria es algo que aún

esperemos que igual nos lo aclare es un proyecto impulsado a la contra

no está a favor la ciudadanía de vitoria que se está informando ahora de cómo va

no elimina un solo coche de la circulación por estas calles este tranvía

no cuenta con un informe ambiental social y salud como piden los técnicos municipales de vitoria con este proyecto en las calles afectadas las aceras

unas veces nos dicen que están enfermos otras veces nos dicen que los van a trasplantar otras veces nos dicen que como son

señora consejera este proyecto va en contra de lo que se aprueba en las cámaras vascas

la estrategia vasca de cambio climático dos mil cincuenta aprobada en esta cámara

ampliando las aceras y la presencia de arbolado en zonas verdes

pasaríamos señorías de una calle amable que se puede hacer la convivencia por ejemplo

del tranvía que tiene que convivir con la circulación del tráfico rodado porque no se elimina un solo coche

lógicamente a los vecinos porque no tiene sentido común en todo este procedimiento no se tiene en cuenta el soterramiento de la vía de renfe aprobado recientemente dice el colegio oficial de arquitectos vasco navarro y le voy a otro dibujo para que la línea rojo es el soterramiento

es esa curva que hacen ustedes para llevar el tranvía a la zona sur que no tiene sentido esa curva tiene sentido si es para ampliar el puente de las trianas

hecho en su día para salvar las vías pero si desaparecen las vías no tiene sentido el puente y no lo digo yo lo dice el colegio de arquitectos no sé y si preguntamos al colegio de ingenieros también lo dirá el colegio de ingenieros porque es un relleno sí

señora consejera dice el colegio de arquitectos cualquier decisión que afecte al tranvía debe supeditarse al proyecto de soterramiento del ferrocarril madrid irún a su paso por vitoria

las conexiones entre los barrios actuales se puede ver perfectamente cómo se puede pasar por todas estas calles genera otro espacio totalmente distinto señora consejera creo que el soterramiento genera un corredor muy adecuado para implantar un tranvía por ejemplo es una propuesta que conecte en línea recta varias zonas de la ciudad desde salburua hasta zabalgana

sin causar estos impactos negativos que provoca este proyecto este proyecto debe cumplir la normativa específica en materia de ferrocarriles

y que también recoge el reglamento del sector ferroviario y así lo reconoce el gobierno vasco

y lo reconoce el ayuntamiento de vitoria en el decreto cuatro de mayo para modificar el plan general de ordenación urbana de vitoria porque este proyecto que tiene

necesita modificar el plan general de ordenación urbana eso que dice señora consejera usted que es

todos sabemos lo que cuesta modificar un plan general no se modifica no es un mero trámite administrativo pero es que necesita modificar tres

tres con lo cual las modificaciones son importantes yo le puedo decir que la última modificación de la plaza santa bárbara tardó dos años en el ayuntamiento de vitoria

sin tener el plan general modificado y esto nunca se ha visto

de los cascos urbanos de pueblos y ciudades pero cuántos y pasan años hasta que el ayuntamiento tiene el valor de entrar a modificar porque siempre

yo creo que esto merece una reconsideración y creemos que no sé un poquito de sentido común esta huida hacia adelante que usted manifiesta nos sorprende

formada informada y creemos que esto requiere

colegios de arquitectos dicen que hay que estudiarlo con el soterramiento sin las asociaciones de vecinos los vecinos

por qué no se espera a eso cuál es el motivo señora conejera nos gustaría que se explique

en junio de dos mil diecisiete eusko trenbide

sin haber empezado sin haberse aprobado en el ayuntamiento de vitoria el modificar el plan general sorprendente de verdad

y dónde está la aprobación del proyecto constructivo

señora consejera nos sorprende la precipitación del gobierno en la tramitación de este proyecto

y luego otra cosa las distancias de seguridad señora consejera le parece normal que haya un metro entre la plataforma entre la

el tranvía y las viviendas un metro usted cree que en un metro se puede hacer vida en una calle señora consejera hay muchas cosas que reconsiderar en este asunto

señora lópez de ocariz de verdad me sorprende que volvamos a traer a este parlamento en menos de una semana dos veces exactamente lo mismo el pasado lunes estuvimos creo recordar bueno yo estuve dos horas creo que ustedes en la comisión estuvieron cuatro porque previamente estuvieron tratándolo con una asociación de vecinos pero bueno en cualquier caso pues repetiremos argumentario entiendo para

desde luego vamos a atender a las competencias que son de cada uno y no me hable usted de lo que debe hacer el ayuntamiento de cuál es el plan de movilidad del ayuntamiento

actuará de acuerdo con lo que diga su pleno municipal en respuesta a lo que se considere y deben estar tan de acuerdo como que firman el convenio para poner en marcha esta actuación y además no solo lo firman

financian por tanto no parece que estemos actuando en contra de la voluntad municipal

en segundo lugar las actuaciones recogidas los acuerdos del pleno municipal de gasteiz hablan de varias cosas como usted dice hablan de la ampliación del tranvía a salburua y a zabalgana hablan de la ampliación

y hablan de la ejecución de un autobús eléctrico rápido una línea de autobús eléctrico rápido una línea circular

que además va a tener conexión con esta ampliación al sur de universidades lo recoge todo a veces

más prioridad a una de las actuaciones o a otras pero todas recogidas

en contra de la voluntad municipal ni siquiera imponiendo un proyecto que el gobierno municipal no quiere ejecutar dicho esto me dice usted que los vecinos las asociaciones de vecinos están en contra bueno conocemos de una asociación de vecinos que ha venido aquí al parlamento y está

recordar que este proyecto ha sido sometido a información ha habido tiempo ha habido trabajo con las alegaciones en algunos casos como siempre en un proyecto se aceptan en otros casos no y también entiendo que los vecinos a los cuales

siempre vamos a tratar de hacerlo de la forma más adecuada posible además usted habla constantemente también lo hizo el pasado lunes

del plan general de ordenación urbana bueno si nos atenemos a la legislación evidentemente tenemos que atender

ferroviaria a las directrices de ordenación del territorio al plan territorial sectorial al plan territorial parcial tenemos muchos planes a los que tenemos que hacer caso y desde luego son limitaciones que le quiero recordar que están dirigidas a garantizar y le leo literalmente lo que dice a garantizar la protección del sistema ferroviario ante terceros

a establecer limitaciones dirigidas al administrador de las infraestructuras ferroviarias habla de distancias limitantes pero en cualquier caso también habla de que estas distancias podrán ser reducidas por la administración siempre que se acredite la necesidad

a la infraestructura ferroviaria y a la seguridad y regularidad en la circulación es decir siempre las limitaciones garantizan

en la normativa más restrictiva por tanto consideramos que no ha sido incumplida la legislación sectorial vigente a la hora de definir el trazado ferroviario sino no hubiéramos continuado

bueno sí es cierto que antes de proceder a la instalación

infraestructura ferroviaria siempre nos referiremos a la primacía de los instrumentos de ordenación territorial sobre la planificación municipal y usted lo sabe perfectamente es decir siempre la legislación ferroviaria la legislación de orden superior

valga la redundancia tiene primacía y es de orden superior a la legislación urbana como usted bien lo conoce y no me cabe la menor duda porque suele estar bien informada de estos aspectos y dice textualmente

artículo siete y diecisiete que los planes generales y demás instrumento generales de ordenación urbanística y sigue

por tanto no podrán aprobarse instrumentos de modificación revisión desarrollo o ejecución de la ordenación territorial y urbanística

que estuviera recogido en el plan general de ordenación urbana sería lo más deseable sí sin embargo el que no esté recogido no significa que la obra en cuestión vaya a ser ilegal sino todo lo contrario además le diría

el convenio firmado el cuatro de mayo de dos mil seis entre la administración general de euskadi y la diputación foral de araba y el ayuntamiento de vitoria gasteiz para la implantación del tranvía en vitoria gasteiz el que ya está implantado y funcionando firmado

rabanera y el señor alfonso alonso dicen

que el proyecto se ejecute y que además era ajustado a la realidad y por tanto se suscribió y en aquel momento

igual que la de ahora luego de verdad señora lópez de ocariz no entiendo que aquello que era legal en el año dos mil seis existiendo

la misma legislación y desde luego algo que hoy exactamente no queda recogido en el plan de ordenación urbana de vitoria gasteiz tampoco lo estaba en aquel momento

por qué lo era por las razones que le he dicho porque siempre la legislación ferroviaria

de la legislación municipal por tanto este ejercicio de verdad de querer intentar echar por tierra una infraestructura que realmente se está observando que atiende

que contribuye a una movilidad mucho más sostenible que trata desde luego de continuar con esa vitoria gasteiz

contribuye a la mejora a una parte de la mejora porque el plan de movilidad es mucho mayor evidentemente no lo entiendo no lo entiendo cuando desde su partido político han mantenido en el pasado

esta situación no es agradable es cierto y también lo decíamos en la comisión que probablemente para

no requiere un tranvía o sí o sí porque depende de las necesidades de movilidad quizá requiera un transporte público y lo tiene

por tanto de verdad no intentemos poner en duda uno la legalidad de la actuación porque

y por supuesto me viene incluso a decir que no existe una declaración de impacto ambiental por favor la declaración de impacto ambiental la tiene que llevar todo proyecto y además se lo leí perfectamente en la comisión una declaración de impacto ambiental que hace referencia específicamente

a todos los impactos ambientales a todos los impactos sociales existe y está en el proyecto constructivo es que no puede ser de otra manera es que no es que esta consejera y este gobierno lo quiera hacer o no lo quiera hacer es que lo tiene que hacer y lo ha hecho por cierto por tanto me voy a quedar

de esta infraestructura que es lo que realmente creo que le importa a la ciudadanía de este territorio y a los que vienen a este territorio a moverse en la última década hemos puesto en marcha muchas actuaciones y en ningún caso desde luego por imposición siempre con el acuerdo municipal y así lo vamos a seguir haciendo este gobierno no va a poner en marcha

en contra de lo que el pleno municipal requiera y en contra de lo que quiera el territorio sería desde luego una barbaridad y no lo vamos a hacer esta infraestructura va con acuerdo municipal
insisto no solo con acuerdo sino con financiación eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

señora consejera no contesta a nada de lo que le planteamos usted cree que en un metro que en un metro esto es un metro en un metro se puede hacer vida en una calle

usted da por bueno esto sencillamente le importa muy poco la ciudadanía de vitoria muy poco la ciudadanía

muy poco por no decir nada hacen un proyecto que carece de sentido común que es básico

que van a reforzar un puente que con el soterramiento decae que no tiene sentido ese puente

alguien conoce el puente de las trianas en lo alto poner una parada intermodal allí

pero señora consejera señora consejera pero quién va a subir allí a montarse en el tren realmente es sorprendente

a eso y que igual requiere de hacer una ampliación del tranvía fíjese no lo sé pero vamos a estudiar los dos proyectos de manera conjunta no de manera atropellada que lo que están haciendo es hacerlo de manera atropellada

se van saltando se van superponiendo los plazos sin terminar uno otro

dónde está señora consejera le repito este proyecto no tiene diagnóstico previo

no existe no cuenta con la participación

de vitoria ese es el acuerdo que nosotros no hemos alterado porque ahí no era prioritario este tranvía

y este acuerdo esto es de la señora tapia y la señora larrion ustedes no han explicado el acuerdo que ustedes tienen porque yo no me atrevo a decir pnv bildu no me atrevo ni a decir eso

el plan de movilidad que prevé como le he dicho canales de participación ciudadana que no han existido sabe que es una zona que no se va a eliminar un coche

es una zona de tránsito de vehículos particulares de elevado en

muy potente de la movilidad y el tranvía qué va a hacer pues hacer un tapón usted cree que caben los sistemas de emergencia en un metro para atender una emergencia usted cree que caben es que se puede haber un espacio puntual pero es que aquí son

de encajonamiento señora consejera este proyecto no figura como prioritario en el plan de movilidad no interesa a los vecinos no interesa a las personas del campus no interesa a los que acuden al departamento de osakidetza les interesa a ustedes a ustedes dos les interesa

señora consejera no estamos facilitando la movilidad de la zona habla de movilidad sostenible no las demandas de la movilidad de la zona le he dicho antes polígonos industriales

no da solución a eso cuál es el problema para y estudiar los dos proyectos conjuntamente cuál es el problema qué urgencia tienen ustedes que no nos la cuentan cuál es la urgencia cuéntenla igual la entendemos que los vecino de san cristobal y adurza cada vez que les

cada siete minutos el tintineo del tren sepan a qué se debe igual es una buena causa además se van a poner dos vagones más sesenta toneladas cada siete minutos

es igual pero qué es esto pero qué es esto señora consejera lo que dicen que va a ser diez millónes de euros se va a convertir en treinta

en hogeita hamar y encima los autobuses que no caben me puede decir esta plataforma con dos vagones más cómo la amplia

señora consejera yo creo que hay demasiada improvisación en todo esto coste no justificado

no está justificado por lo tanto señora consejera no creo que estén pensando en la movilidad del barrio ni en la movilidad de vitoria creo que están pensando en otras cosas

pero creo que es más la necesidad de hacer obra al precio que sea

de verdad yo sí que no entiendo su empecinamiento en decir que ni cabe ni sirve ni hemos hecho proyecto ni en enseñarme un metro que por cierto ya sé cuánto es por favor si queremos hacer un poco teatrillo pues estupendo pero

lo que no le voy a tolerar es que diga que hacemos las cosas sin proyecto eso no se lo voy a tolerar porque quien viene aquí a decir que los autobuses no caben que las emergencias no están estudiadas que el

cuando no estamos actuando de espaldas al ayuntamiento cuando estamos trabajando con unos diseños y unas actuaciones por las calles de acuerdo con el ayuntamiento por favor

de forma un poquito más seria me habla de atropellos se lo dije

se pone en marcha el actual trazado del tranvía y ya estaba prevista la ampliación

cuando once años después estamos hablando de ejecutar la infraestructura no parece muy atropellado este plazo insiste una y otra vez en que no existe diagnóstico previo hombre después de once años me da la impresión de que algún diagnóstico existe el soterramiento de las vías del tren

de la alta velocidad en gasteiz se lo expliqué el lunes con una parada que va a facilitar la intermodalidad pero no solo la estudiamos nosotros como gobierno vasco porque está el tranvía es que se ha planteado junto con adif en el proyecto de soterramiento y parece que

porque de verdad tantos ingenieros de caminos para analizar un proyecto pues algo han debido de pensar me da la impresión de que algo han debido de pensar y han debido

aceptable no le voy a decir que es la panacea pero medianamente aceptable parece que ha podido ser usted me saca una serie de profesionales que dicen no sé qué cosas pero estos proyectos no los hace el primero que pasa por la calle son profesionales que lo ejecutan y casualmente

estamos trabajando con otra institución que también tiene profesionales desde luego a lo que yo respeto muchísimo me habla usted de que este acuerdo no es ni siquiera con el ayuntamiento

ejecutar esta obra en sí misma yo desde luego no tengo mucho tiempo para ejecutarla

y no solo con el municipio con el ayuntamiento de vitoria gasteiz sino también con la diputación foral de araba luego vamos a ser un poquito serios y vamos a decir lo que estamos diciendo

habrá problemas seguro bondades le voy a hablar exactamente de aceras peatonales la superficie actual útil de aceras son

la superficie útil de aceras peatonales es de diez mil metros cuadrados es que hemos hecho los números verdad

pero es que lo que hemos ganado es en plataforma de bidegorris

por tanto la movilidad no solamente hay aceras hay tranvía hay bidegorris zonas verdes

así por dar unos datos la situación final de la parada en la universidad se ha hecho un pequeño cambio que hace que

la implantación del tranvía induce una disminución de transporte privado y una disminución de ruido

y usted sabe perfectamente que un estudio de demanda de transporte público siempre se suele quedar corto porque la demanda inducida una vez que aparece el transporte público siempre es mucho mayor que la previsión luego es cierto que unos determinados vecinos pueden tener una dificultad pero el conjunto de la ciudad es lo que tenemos que estudiar y los estudios de demanda y las previsiones existen usted lo sabe usted lo sabe y desde luego existen no solo ahora sino desde el dos mil dieciséis y el proyecto conjunto con el soterramiento también existe

que el puente de trianas tiene que seguir funcionando exista el soterramiento o no lo sabe usted pero puede utilizarlo cuantas veces quiera que yo le responderé cuantas veces usted me pregunte eskerrik asko

la plataforma logística arasur es una infraestructura

una participación del diez por ciento es un accionista menor y sin embargo en dos mil quince

para la cual en el presupuesto de este año dos mil diecisiete se dedican

todo el dinero que se dedica a una inversión tiene que tener una rentabilidad y mi pregunta es cuál es la rentabilidad que pretende conseguir el gobierno vasco con esa inversión

pero no son la misma ni mucho menos en primer lugar decíamos la sociedad arasur

de propiedad mayoritariamente privada donde el gobierno vasco tiene un capital de un diez por ciento desde el inicio y los participantes son además del gobierno vasco kutxabank

gobierno vasco sí diputación foral de álava y el ayuntamiento de ribera baja y lo que ponemos en marcha en colaboración con

acceso por carretera si bien el acceso ferroviario pasa muy cerca de la misma y lo que pretendemos es contribuir a revitalizar

de bilbao en este caso que también está implicado en el convenio de tal manera que exista en estos momentos una zona ferroviaria que nos permita hacer ese tránsito de carretera a ferrocarril y además unirlo con un puerto es decir

que nos permita esa intermodalidad absoluta eso por una parte mejora desde el punto de vista de transporte

contribuye que la competitividad de la misma sea mucho mejor

tal como usted me decía en la propia pregunta podamos recuperar las inversiones que hemos hecho todas las instituciones no de forma directa pero sí a través de la mejora de la competitividad

señora tapia que arasur y la terminal van juntas es una evidencia y que la terminal es para dar servicio a arasur también lo es

el ochenta y ocho por ciento del capital de esa empresa es privado el ochenta y ocho por ciento es privado y en concreto la mitad de ese capital privado pertenece a merlin parques logísticos sa que es una empresa radicada en barcelona filial de una socimi madrileña para quien no sepa lo que es una socimi

que tributa el impuesto de sociedades al cero por ciento y que cuenta con un noventa y cinco por ciento de bonificación en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

estamos dedicando dinero público a comprar unos terrenos a cambiar los usos del suelo y a construir una infraestructura que solo va a revitalizar a una empresa privada no a una comarca ni a una zona a una empresa privada que además

entonces yo me pregunto dónde está el interés público cuál es la rentabilidad económica se lo vuelvo a decir para la ciudadanía vasca de esta inversión que se está haciendo con dinero público se están dedicando recursos públicos a tratar de reflotar una empresa privada que tiene una deuda de más de cincuenta millónes de euros que nunca jamás ha tenido beneficios

y cuyo volumen de ventas ha caído un veinticuatro por ciento entre dos mil catorce y dos mil quince

actividad de arasur que no factura más de dos millónes al año

han cuantificado en el gobierno vasco vuelvo a repetir el impacto económico que tendría la nueva terminal en las cuentas de esta empresa existe ese estudio

en resumen le parece una buena gestión dilapidar el dinero público para ayudar a enjugar las pérdidas de una sociedad privada que ni tiene beneficios ni paga impuestos
aun a sabiendas de que es económicamente inviable esa empresa muchas gracias eskerrik asko becerra jauna erantzuteko

señor becerra ya se lo decía al principio no conviene mezclar las cosas

privada el gobierno vasco tiene el diez por ciento en esos pabellones que existen ahí y en ese funcionamiento ahora bien la terminal que se pretende poner en marcha

va a ser propiedad pública por eso hemos firmado públicamente ese convenio

independientemente aunque esté ubicada allí va funcionar independientemente de lo que es la plataforma logística como lo hará

por tanto lo que garantizamos es que los públicos que invertimos dinero

de este país hacia el modo ferroviario y de esa manera facilitar su tránsito hacia el puerto de bilbao ese es el objetivo de la actuación del convenio

enjuagar pérdidas dilapidar dinero público y cosas similares

arasur es una cosa y lo que es la terminal ferroviaria la terminal intermodal ferroviaria que se ubicará

es otra cosa bien diferente está ubicada en el mismo terreno sí son la misma cosa no y son sociedades diferentes que no tienen nada que ver la una con la otra

no hay dinero no se trasvasa de una sociedad a otra no confundamos los términos

una tramitación simplificada y una tramitación ordinaria en el caso que nos ocupa entendíamos que se trataba de un proyecto muy concreto de un único pozo y que podía realizarse de forma simplificada eso era nuestra opinión pero sin embargo sabíamos que podíamos tener sobre la mesa

con una tramitación ordinaria además el ministerio de medio ambiente así lo ha considerado y además entendemos que puede ser debido a que instituciones tan relevantes como el ayuntamiento de gasteiz y la diputación foral de álava habían solicitado además hacerlo de forma ordinaria

la verdad es que el estudio que se había realizado de impacto ambiental era bastante más exigente que lo que podía ser una tramitación simplificada por tanto no nos queda nada más que ejecutar de la mejor manera posible ese estudio con todos los detalles que se nos han pedido hacerlo de forma ordinario sí es cierto que nos llevará más tiempo pero entendemos que tampoco se ha hecho

que exigían la denegación de los permisos de investigación no ha sido ese el caso sino que se nos ha dicho hagan ustedes una tramitación ordinaria más exacta más concreta y desde luego que nos va a llevar más tiempo como no tenemos ninguna voluntad

toda esa exigencia de hacer una tramitación ordinaria eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea otero jauna zurea da hitza

una roca reservorio con valor de permeabilidad por debajo de cero coma uno milidarcys es un reservorio no convencional sus estudios dicen que la permeabilidad está por debajo de eso así que haga usted el favor usted que tanto le gusta el rigor de ser rigurosa

es que en cuanto a la documentación presentada por shesa cumple con creces

y sobrepasa en dimensión y en rigor lo habitual en estos casos porque precisamente queremos ser rigurosos en la elaboración de los informes correspondientes y la sociedad ha sido escrupulosa en un apartado como es el medioambiental y la dirección de energía a su cargo cuando se le pidió opinión concluía el informe indicando que no son esperables

significativas pero muy lejos de esto de esta postura el ministerio en la resolución que les manda la casilla uno resume las principales carencias detectadas al proyecto y dice la instalación de la conducción para abastecimiento de agua es susceptible de afectar

de que el proyecto susceptible de generar un impacto radiológico significativo para los trabajadores y el medio ambiente la necesaria ampliación de información se hace extensible a otros aspectos de la documentación impactos medidas plan de vigilancia ambiental etcétera

la ausencia de un plan de contingencias para incidencias medioambientales significativas eta gabezi askoz gehiago aipatzen dira

honela amaitzen du ebazpenak esaten du teniendo en cuenta todo ello y a propuesta de la dirección general de calidad y evaluación ambiental este ministerio resuelve

vaya a producir impactos adversos significativos vaya a producir impactos adversos significativos

ampliación e información eta tramitea ohikora pasa ezazu es decir

y lo que estamos buscando no es hacerlo a toda costa sino precisamente hacer una declaración de impacto ambiental que nos diga si realmente

exploratorio va a haber o no impactos ambientales y de qué características van a ser

y desde luego vamos a hacerlo de la mejor manera posible aunque sí es cierto que pensamos que en este caso se podía haber hecho simplificado nos dicen que no acatamos

baten ondoren tenemos que decir señora consejera que el informe diagnóstico que usted presentó el pasado treinta y uno de mayo en la comisión de empleo y políticas sociales es un informe realizado a raíz de una iniciativa del partido popular

y nos abstuvimos porque entendíamos que ya existía ese diagnóstico proporcionado por los múltiples datos existentes que su predecesor en las responsabilidades que ahora usted ostenta ya había elaborado un informe

técnica y por otra parte también a parte de instar al gobierno vasco a elaborar un informe en el plazo de cinco meses se instaba a que posteriormente a la elaboración de ese informe en el plazo de un mes se tenían que establecer los mecanismos más adecuados para el estudio de dicho informe

se procedería a la revisión del sistema desde el grupo popular se lo hemos reiterado en varias ocasiones y se lo vuelvo a reiterar hoy en esta

bideratzea eta ekartzea legebiltzarrera eztabaidatzeko consideramos desde el grupo popular como le decía que lo más adecuado es que ya de una vez por todas

a esta cámara un proyecto de ley de modificación de la normativa de la renta de garantía de ingresos ya le decía los primeros debates a esta cámara que trajo el partido popular tenían que ver que la modificación de la normativa de la rgi que es a este al que nos estamos refiriendo y con la reforma de lanbide

con las preocupaciones de los ciudadanos preocupaciones que tienen que ver con la gestión de las ayudas sociales con las deficiencias en la gestión en el sistema de las ayudas sociales y también con la consecución de la empleabilidad de

en la activación de las personas no solo que perciben ayudas sino las personas

irtenbideak eta konponbideak gobernuaren aldetik decía que queremos otra vez aprovechar esta oportunidad para pedir soluciones a este gobierno

la pasada legislatura se la pasaron ustedes en blanco soluciones efectivas

empezando a reconocer la evidencia ya que los datos obviamente hablaban por sí mismos y como le decía anteriormente y se lo he repetido en numerosas ocasiones ya teníamos

toña esta legislatura empieza reconociendo el problema pero les falta pasar a la acción siguen sin actuar señora consejera y señores del gobierno

que empezó negando pero como le digo faltan poner soluciones efectivas y arreglar el problema como corresponde nos han acabado por dar la razón señora consejera no sé si esto les hace mucha gracia pero

el partido nacionalista vasco que se pasó la legislatura anterior en blanco

tengo que recordar la iniciativa planteada por el partido popular la proposición de ley ambas dos iniciativas legislativas no tomaron en consideración no se tomaron en consideración en esta cámara y ahí se perdió una oportunidad de abrir el debate en relación a esta cuestión y sencillamente no hubo oportunidad de abrir este debate porque

de iniciarlo espero que ustedes obviamente

y ya adopten las medidas necesarias y las soluciones que requiere este problema y la magnitud también de este problema estamos siempre ante nuevas maniobras dilatorias usted me va hacer referencia al plazo de ese mes y me va a señalar seguramente que usted ya ha cumplido elaborando ese informe diagnóstico

algunas de las propuestas además que se plantean coinciden con propuestas que el partido popular presentaba en esas iniciativas y la ilp ustedes hablan de no computar algunas

patrimonio como que llevan que no se pueda percibir la rgi eso nosotros lo llevamos en la iniciativa legislativa popular plantean en reducir el tiempo de empadronamiento nosotros planteamos aumentarlo

es decir ustedes están claramente perdiendo el tiempo las múltiples deficiencias tienen que ver con cuestiones de gestión que ustedes han puesto de manifiesto en su informe hablamos de los ciento treinta y dos millónes de euros de cobros indebidos de los que solo han recuperado veintiséis

que es un problema estructural que según se hagan nuevas revisiones aflorarán nuevos cantidades de cobros indebidos me imagino que la misma afirmación valdrá para el fraude para las irregulares y para los abusos en la medida que usted también

no solo aflorarán nuevos cobros indebidos pagos indebidos si los imputamos a lanbide sino también nuevas situaciones de fraude abusos irregularidades

problema estructural de lanbide y como es un problema estructural de lanbide vienen con la solución de eximir del pago de los cobros

o fraude como ustedes señalan es decir en este punto concreto ustedes con esta propuesta específica también no quieren asumir su responsabilidad por acabar voy a hacer unas referencias también en las que se constatan

de escuchar la comparecencia del mismo en esta comisión

no existe un modelo único de atención la atención es diferente según en la oficina en la que se acude

la realidad que constatan los informes en este caso del ararteko que me imagino que también le otorgará a usted una cierta credibilidad

se detallan también carencias formativas del personal es que se le dan unos cursos teóricos al personal

señalan que son absolutamente insuficientes para hacer frente a las necesidades que se les plantean en las oficinas de lanbide

informáticas se habla de la escasa funcionalidad de estas herramientas y los pocos avances que se han dado en estos soportes informáticos

se habla por supuesto del amplio margen de mejora que existe en relación a los convenios de inclusión a la atención personalizada por cierto cuando usted nos habla entre las propuestas de que se dé contenido a los convenios de inclusión y que se ponga una persona guía a cada persona perceptora de las ayudas sociales pues si esto ya está previsto en la ley

no han querido dotar contenido a los convenios de inclusión no han querido hacer un seguimiento de las acciones de orientación formativas

pero por una ineficaz gestión y por la falta de herramientas que tiene lanbide a tenor de los datos que estamos conociendo en los sucesivos informes

no es posible hacer un seguimiento de las previsiones de la propia ley señora consejera para acabar no nos podemos permitir el lujo de que ustedes sigan

nos diera la solución creemos que ya es hora de que ustedes por una vez por todas asuman su responsabilidad

demasiadas novedades nos hablan de controlar el requisito de la residencia efectiva eso ya era un requisito que estaba establecido en la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social y usted ya sabía que ahí había problemas y lo sabía en la pasada legislatura por tanto no nos vengan ahora

por lo tanto les instamos señora consejera y por eso le preguntamos por qué motivo está retrasando usted la reforma de la rgi de lanbide en esta legislatura

egun on guztioi no es que me aburra el tema lo que el tema

y además creo que le preocupa a toda esta cámara la solución

el sistema de garantía de ingresos el sistema de protección que en este país ha dado resultados importantes de cara a reducir la pobreza

se tiene que llevar a cabo mediante el consenso y el trabajo de esta cámara utilizando como herramienta lanbide vayamos a conseguirlo lo que me aburre en ocasiones es que siempre se haga el mismo discurso sin también tener en cuenta las iniciativas que este gobierno

que yo en este momento no puedo solucionar me ha llamado la atención la pregunta porque entendemos que no se está produciendo ningún incumplimiento ni ningún retraso en las cuestiones que usted me plantea estamos cumpliendo con los plazos marcados hace seis meses al inicio de esta legislatura y estamos trabajando en continuas mejorar de la rgi en la gestión de lanbide

de servicios sociales en la que presentamos unas iniciativas para mejorar en el corto plazo lo que era la gestión de la renta de garantía de ingresos que usted me comentaba que por qué tenía tanta prisa a la hora de llevar a cabo o de presentar estas iniciativas cuando teníamos pendiente un debate mucho más intenso y sosegado

que una cuestión era lo que tenía que ser la reforma de una ley y otra cuestión era lo que era la gestión y la mejora continua en la que todas las organizaciones tienen que estar

las propuestas que hizo las hizo para mejorar una serie de cuestiones que entendíamos iban a favorecer la relación con los usuarios y con los trabajadores y vamos a favorecer esa mejora en el ámbito de la informática en el ámbito de la formación en el ámbito de las relaciones no sé si de forma intencionada o no pero se mezclan dos

sobre la modificación de las ayudas sociales y por otro lado la de la proposición de ley del año dos mil diecisiete sobre un plan de reforma de lanbide

también se especificaba en ese pacto que tendríamos que contemplar modificaciones

para adelantarnos y responder a las situaciones de pobreza revisando las unidades de convivencia también

evitando que se produzcan situaciones de cronificación y eso es en lo que estamos

este diagnóstico en un plazo de cinco meses y eso también lo hemos cumplido señora garrido el plazo finalizaba el quince de mayo y yo solicité

esa comisión se celebró el treinta y uno en la que se presentaron diversas propuestas de mejora y no solamente algunas relativas a lo que es la gestión sino unas

como tienen que ser la determinación de las unidades de convivencia para proteger especialmente a las familias con hijos los avances en la cuantía la agilización de la certificación de la residencia efectiva

las mejoras también en la valoración del patrimonio también se han propuesto mejoras en el ámbito de los estímulos al empleo y también la implicación de la empresa ordinaria en la generación de oportunidades de empleo

y esta iniciativa la hemos cumplido el treinta y uno de mayo yo presenté estas iniciativas en esta sede parlamentaria con el objetivo de iniciar

versión que estime más adecuada este parlamento el trabajo para llevar adelante un trabajo serio

llegar a un acuerdo unánime si pudiera ser para mejorar y consolidar el modelo del que nos hemos dotado y en relación a la segunda propuesta

sobre el plan de reforma de lanbide se nos instaba a elaborar en un plazo de seis meses

en todo este tiempo también hemos estado trabajando en la reforma y modernización de lanbide para dotar al servicio de herramientas que permitan reforzar las funciones de orientación formación e inserción en el mercado y en breve plazo pediremos también la comparecencia para explicar en qué

iniciativas que queremos llevar adelante para mejorar la gestión de lanbide y para modernizar ese servicio

y se desarrollan diversos apartados o ejes para la mejora de sus servicios son propuestas que presentaremos como le comento en los plazos marcados que están bien trabajadas contrastadas y van a ser eficaces y destinadas a un amplio consenso para la apuesta y para la gestión de un empleo y de un empleo de calidad lanbide tiene que ofrecer

y personalizado a cada persona demandante de empleo integral porque acompaña a cada persona durante el proceso de búsqueda de empleo asesorándole orientándole asistiéndole con diferentes acciones de formación y personalizado porque se diseñan planes individuales adecuados a cada perfil queremos que lanbide contribuya a lograr el pleno empleo un empleo además que sea estable y de calidad

a quienes están en situación de desempleo o a quienes desean incorporarse o están trabajando y quieren mejorar

que quieren cubrir puestos de trabajo y que necesitan asesoramiento y apoyo para la creación del empleo lanbide ofrece para ello una atención personalizada directa y de calidad mejorar las oportunidades de conseguir empleo estamos incluyendo nuevas herramientas en esa tarea como es el caso de future lan

de búsqueda de empleo facilitando herramientas como formación técnicas de búsqueda de empleo prácticas en empresas asesoramiento personalizado e intermediación pero además en marzo presentamos también en esta cámara una serie de medidas de carácter inmediato como le comentaba anteriormente con el objetivo

tengan respuestas más rápidas a la hora de realizar los trámites pertinentes y al mismo tiempo abrir a toda la ciudadanía vasca este sistema para su mayor conocimiento los objetivos de estas medidas de carácter inmediato que se presentaron en su día son claros y con un horizonte en el corto plazo

adelante interno mejorando los sistemas de gestión control e información esta recomendación que nos hacía el ararteko en cuanto a los sistemas de informática que tenemos que mejorar ya lo estamos trabajando para adecuarnos y para mejorar nuestra formación y para mejorar nuestros sistemas de información segundo

por parte de la administración también estamos trabajando hemos reducido el periodo medio de tramitación de las rentas de garantía de ingresos de cien a cuarenta días tenemos que seguir mejorando pero estamos en ello tercero el público en general debe ser objeto de una información ágil que persiga la comprensión del modelo y sus efectos en la sociedad actual estamos trabajando en una lectura fácil

en publicar como hemos publicado los criterios de tramitación de la renta de garantía para garantizar la transparencia y para que los perceptores sepan cuáles son sus

hemos identificado esas actuaciones prioritarias que ya enumeramos en aquella comisión estamos trabajando constatando que la

es una cuestión que nos preocupa a todos y nosotros como gobierno estamos ocupados en la búsqueda de estas medidas que nos sirvan para ayudar

ustedes con las iniciativas parlamentarias también nos han trasladado su preocupación

y por eso desde el departamento que tengo el honor de ostentar estamos llevando a cabo las iniciativas que tenemos y entendemos que son a corto a medio y a largo plazo las que tenemos que poner en marcha

pero cuando usted me dice que no hemos hecho nada cuando usted me dice que presentamos rápidamente iniciativas y que nosotros

sosegado de la ley a veces me confunde señora garrido porque nosotros tenemos intención de seguir trabajando mejorando lo que es la gestión de la renta de garantía de ingresos que tiene que ir de una forma complementaria a lo que puede ser una reforma más integral
y en profundidad de la ley pero no nos tenemos que para solamente en eso hay que ir avanzando día a día mejorando la calidad del servicio que presta lanbide eskerrik asko artolazabal andrea garrido andrea zurea da hitza

operaciones de maquillaje parches pero aquí lo que necesitamos son reformas integrales reformas en profundidad viendo los datos que tenemos

sus objetivos de empleabilidad tanto de las personas perceptoras como las personas desocupadas y ahí están también las cifras de intermediación el propio informe del ararteko alerta claramente de que hay que dotar de contenido a los convenios de inclusión

hay un amplio de mejora en todo lo que tiene que ver con la activación de las personas que están en el sistema

nuevamente para cuándo las soluciones señora consejera para cuándo va a asumir este gobierno de una vez por toda su responsabilidad pero no planteándonos

mejoras que son meras operaciones de maquillaje que son cuestiones

en integridad y en la profundidad que requiere la solución a este

va a cumplir este gobierno con su calendario legislativo señora consejera es que en el calendario legislativo que nos ha enviado este gobierno la previsión de la modificación de la normativa de la renta de garantía de ingresos

lo va a cumplir o va a pasar como la pasada legislatura que la final hubo que meter el acelerón incluso atropellando los plazos

de ley como se aprobaron porque nosotros desde luego no tenemos mucha confianza en el cumplimiento por parte de este gobierno en cuanto al calendario legislativo se refiere y a los hechos me remito por no citar aquellas leyes que estaban previstas que se remitieran a esta cámara

claro es que usted me da la sensación de que quiere también

en la cámara en la búsqueda de ese consenso pero es que la principal responsabilidad de plantear una reforma legislativa ya que ustedes

pues no aprovecharon la oportunidad la pasada legislatura es de ustedes claro usted me dice el discurso

el que llevó a que del año dos mil nueve a dos mil doce la legislatura de patxi lópez ya se introdujeran previsiones

en la normativa que usted nos la plantea también ahora como novedosas es que ya se planteó que se incrementaran las revisiones es que ya se planteó que por rechazar un empleo

es que ya se planteó una unidad de control que ustedes ahora se plantean reforzar es que todas esas cuestiones se introdujeron en la normativa y en el sistema por iniciativas del partido popular que llevaban mucho tiempo presentando en esta cámara me habla también

hablamos de la normativa y hablamos de la gestión sí es que son dos caras de la misma moneda es que usted misma

que no se está gestionando bien las previsiones que lanbide no está haciendo

de las previsiones normativas es decir cuando usted nos plantea nuevos controles de la residencia efectiva pero si el empadronamiento y la residencia efectiva ya es un requisito que hay que cumplir en la ley ustedes si no están verificando que se está cumpliendo ese requisito

de gobierno que tienen sobre lanbide y el servicio vasco de empleo claro me dice que están pero se siguen constatando las mismas deficiencias

en los sistemas informáticos se siguen constatando deficiencias de formación del personal que se lo he dicho antes es que el personal dice es que no tenemos herramientas es que se nos dan unos cursos de una serie de horas absolutamente insuficientes e inadecuados para luego las cuestiones técnicas

en la gestión y en la tramitación de esta prestación y por no hablar

las personas se cronifican en el sistema señora consejera si usted lo sabe

y formación por lo tanto nosotros creemos que ustedes tienen que asumir su responsabilidad

esa es la forma de abrir el debate en esta cámara y por lo tanto no dilaten las soluciones efectivas que requiere la magnitud de un problema estamos hablando de empleo estamos hablando de que ustedes uno de sus eslóganes en la campaña electoral y en los discursos del lehendakari ha sido la mejor política social en empleo pues pónganse

y que lanbide funcione como debe de funcionar y que cumpla los fines que tiene encomendado
en la ley ya de una vez por todas que ya es hora eskerrik asko garrido andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

señora garrido de verdad yo no entiendo porque después de todas las cuestiones que le he planteado de todas las iniciativas que estamos poniendo encima de la mesa de todas las iniciativas y cuestiones y herramientas que estamos

gobierno no hace nada creo que ya su discurso

lo que desde la legislatura pasada llevan diciendo y que de verdad señora garrido ya hemos pasado la página estamos en otro momento estamos haciendo otra serie de cuestiones y creo que lo que tenemos que hacer todos es seguir avanzando hemos presentado en el plazo que se nos ha dicho por parte de este parlamento

modernización de lanbide y lo vamos a hacer entonces también hemos definido que según el calendario legislativo para nosotros vamos a

y lo vamos a cumplir si hemos venido cumpliendo las cuestiones anteriores en el plazo y la forma por qué no confía en nosotros que vayamos también a cumplir con lo que es la aprobación de esa ley nosotros hemos hecho el trabajo

yo no me voy a escapar de esta responsabilidad que tengo pero ahora nosotros lo que hemos hecho ha sido

teníamos que hacer y ahora son ustedes como parlamentarios los que van a decidir cómo son los trámites

ya impulsaremos nosotros lo que tenemos que impulsar porque somos los más interesados en que

esta cuestión se cierre y se cierre de una forma ordenada antes en la legislatura pasada el debate de la renta de garantía de ingresos no se

profunda porque había cuestiones electorales que iban a de alguna forma perjudicar o no

no permitir un debate sosegado ahora estamos en una época tranquila

que es propicia para llegar a acuerdos y yo señora garrido de verdad

gran política en este ámbito y en esta materia también cuando habla del ararteko

estamos en el año dos mil diecisiete las recomendaciones que el ararteko ha propuesto en su informe y que además tenemos una relación tanto a nivel político como técnico estrecha han sido recogidas en parte en las quince propuestas de modificaciones que hemos hecho

también me dice que la formación de los trabajadores de lanbide no es la adecuada cierto para eso hemos presentado un plan y vamos a trabajar en un plan de formación de esos trabajadores

una de las cuestiones importantes que también hemos implantado es la de realizar encuestas de satisfacción anuales dentro de lo que son los propios perceptores usuarios de los servicios de lanbide y el ochenta y cinco por ciento de las personas que son atendidas por lanbide declara estar satisfecha con la atención que recibe todo es mejorable y desde luego en eso estamos pero el ochenta y cinco por ciento de las personas más de mil ciento veintitrés personas a las que se les realizó la encuesta que el trato que reciben por parte de los trabajadores y por parte del servicio de lanbide servicio de empleo público de euskadi es satisfactorio el grado de satisfacción ha aumentado

y especialmente positiva es la valoración que hacen las personas usuarias de lanbide de la amabilidad del personal un apartado que ha obtenido una calificación de ocho coma diez puntos la atención presencial con siete coma seis y el dominio de la materia por parte de los profesionales que les atienden del siete coma cinco por tanto que tenemos mucho que trabajar que tenemos mucho que hacer pero que todo todo no lo estamos haciendo tan mal el estudio de satisfacción como le decía incluye que estamos mejorando y más de la mitad de las personas atendidas considera que los servicios que ha tenido y que

es verdad que este gobierno tiene el objetivo de trabajar en la reforma de la renta de garantía de ingresos y en la modernización del servicio vasco de empleo y en ello estamos señora garrido

en el primer cuatrimestre del año dos mil dieciocho esa es nuestra intención y espero que cuente con el apoyo de esta cámara para poder conseguirlo eskerrik asko artolazabal andrea

señora kortajarena el servicio público de teleasistencia es una apuesta clara y evidente de este gobierno y desde que a mediados del año dos mil once pasó a ser titular en la gestión y prestación de este servicio

trabajando para garantizar una notable mejoría de la calidad de vida de nuestras personas mayores somos un modelo en la unión europea referente en el estado y también sabe usted perfectamente que otras comunidades autónomas se han acercado a nosotros cuál es nuestro modelo creo que es preciso contextualizar la respuesta que ahora le quiero ofrecer

de la eficiencia en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación

lo que se ha plasmado en el último expediente de contratación adjudicado en octubre del año pasado y que supone una apuesta en un modelo centrado en la persona

esta nueva adjudicación pretende homogenizar la prestación de este servicio en los tres territorios desde el año dos mil once las empresas que prestan el servicio mantienen una colaboración con dya

continuando la colaboración que ya existía cuando las diputaciones forales eran las encargadas de gestionar el mismo

para realizar la cobertura nocturna del servicio en bizkaia en horario de diez de la noche a ocho de la mañana algo que ya estaba previsto en los pliegos de licitación

en la valoración de la oferta que ha resultado adjudicataria

y además percibiéndolo como una mejora para el colectivo de las personas oficiales de teleasistencia que dejaban de hacer las noches asimismo es necesario puntualizar que los aspectos laborales son competencia exclusiva de las empresas adjudicatarias

de transformación garantizando la calidad del mismo el conflicto laboral tiene su origen principalmente en la nueva organización del servicio de noche que lo va a desempeñar

en los territorios de araba y de gipuzkoa no se van a producir despidos y solo se va a tratar de la reubicación de estas personas en los turnos de día

en la prestación del servicio nocturno es la que ha hecho

quiera llevar adelante esta homogenización se trata de racionalizar los recursos el colectivo de trabajadores deja

el que las cosas se hagan bien no quiere decir que no sean mejorables y el que las cosas se hayan venido haciendo bien no quiere decir que algunas medidas que se tomen no impliquen que esa situación vaya a peor ez gara gauza txikietaz ari kontu

con ese modelo que usted dice de modelo de atención centrado en la persona

una mejora del sistema y del servicio reconocemos el trabajo de los profesionales que lo llevan haciendo creo que es un trabajo que ha demostrado y ha validado el modelo porque además así lo hacen los propios ciudadanos y ciudadanas de este país porque han pasado

cuarenta y tres mil como usted bien ha dicho en este momento por tanto el modelo funciona y el modelo funciona bien

afianzar el modelo el que se produzca la homogenización y que en bizkaia la dya lleve a cabo el trabajo que lo lleva realizando en araba y en gipuzkoa no significa una merma de la calidad para nada

yendo en contra de las condiciones económicas ni laborales de los trabajadores simplemente lo que se hace es incluso además así se valoró en el expediente

mejorando la calidad del servicio desde luego lo que nosotros pretendemos es que esto
se solucione a la mayor brevedad eskerrik asko artolazabal anderea gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa miren larrion ruiz de

también en declaraciones públicas la actual rectora nekane balluerka leo textualmente decía

también tenemos problemas de accesibilidad en algunos centros y queremos mejorar la prevención de riesgos laborales

y para eso tenemos que pasar todos los puestos que están financiados con cargo al contrato programa

y de personal investigador también queremos incrementar los pas en técnicos de laboratorio

y también en técnicos informáticos de los que tenemos mucha necesidad somos el principal agente investigador de este país la upv genera el sesenta y cinco por ciento del conocimiento

y mejorarla la crisis ha producido efectos negativos en la investigación hay que recuperar el ritmo de crucero de la inversión para la investigación y también quiero recordar diferentes compromisos asumidos por el lehendakari

reconoció la necesidad de facilitar y mejorar las condiciones de los equipos de investigación universitaria y recordó que el gobierno vasco se ha comprometido en incrementar en un cinco por ciento cada año

es una de las interpelaciones que hacemos la forma en que plantea su gobierno su departamento facilitar y mejorar esas condiciones y la forma en que va a repercutir si es que lo va a hacer ese incremento en ayudas si se va a destinar una parte directamente o mediante convocatorias competitivas en su departamento o en otros departamentos

estamos en el inicio de una nueva etapa en el gobierno vasco también en la universidad esto nos da la opción de mirar al futuro y afrontar los nuevos retos es tiempo de compromiso

los objetivos establecidos para la evolución del sistema universitario vasco como la financiación asociada a cada uno de los apartados que aborda dicha plan en base a la ley tres barra dos mil cuatro en este sentido el plan universitario dos mil quince dos mil dieciocho es el tercer plan integral con el que cuenta el sistema universitario vasco desde su creación en dos mil cuatro

para desarrollar las acciones estructurales y los objetivos específicos de nuestro sistema de nuestras universidad y de la upv ehu para este periodo

el plan universitario es el instrumento para la ordenación del sistema universitario vasco así es este plan determina objetivos y prioridades para su periodo de vigencia

el plan universitario garantiza un modelo de financiación suficiente para el cumplimiento

además cabe mencionar que la experiencia del plan universitario es larga más de dos lustros en los que se ha trabajado y acordado la planificación y financiación del sistema

periodos rectorales esta situación permite una estabilidad de las políticas los objetivos y las acciones más allá de gobiernos o rectorados así

como sabe el último de estos acuerdos tuvo lugar el año dos mil catorce y dio paso al plan universitario vigente en este momento que por cierto estará vigente hasta diciembre de dos mil dieciocho es decir quedan objetivos y acciones por cumplir

estas labores son la docencia la investigación y la gestión como digo estos contrato programa son subvenciones acordadas

pues bien tengo que decir que el análisis y la evaluación de los indicadores que se fijan para medir y seguir la consecución de las acciones y objetivos planificados y acordados ha sido satisfactoria hasta el momento evidentemente la planificación de nuevos objetivos y acciones deberá ser objeto de reflexión debate y acuerdo

para elaborar el próximo plan universitario para el periodo dos mil diecinueve dos mil veintidós

un enfoque que está en línea con el que realizan los países con políticas científicas de primer nivel en lo que se refiere a la financiación a través del plan universitario del apartado de investigación y transferencia de la upv ehu

el contrato programa contempla una inversión de setenta y cinco coma cinco millónes de euros para el periodo dos mil quince dos mil dieciocho de ellos quince millónes son destinados a promover e incentivar la investigación básica y aplicada y de excelencia

uno coma tres millónes a divulgación diecinueve millónes a la biblioteca y el resto se destina a otros programas vinculados a la calidad y la internacionalización de la universidad pública en resumen cada año este gobierno destina de media diecinueve millónes de euros de forma directa al apartado de investigación

a la universidad pública que completa la aportación ordinaria para salarios de personal docente e investigador

en el resto de universidades del sistema universitario vasco en este caso la cifra aumenta hasta los ciento tres millónes de euros es decir euskadi invierte en cada uno de los cuatro años de vigencia del plan

en las universidades y quiero recalcar que esta inversión no es competitiva tal y como trasladé en mi comparecencia al inicio de la legislatura esan nuen bezala bikaintasunaren espezializazioaren eta nazioartekotzearen

como claves de éxito de nuestro modelo de educación universitaria y de política científica vasca para la consecución de estas apuestas la pieza clave de nuestro modelo está sustentando en nuestro sistema universitario vasco del que la upv ehu es la pieza fundamental

que ayer en el consejo de gobierno de la upv cuando se aprobaron los presupuestos

sea la propia rectora la que tenga que reclamar al gobierno vasco más dinero para la universidad porque no cumple los acuerdos firmados entre los dos lo grave realmente

tenga que decir que se tiene que aumentar la financiación y que no se esté aumentando

que hace el gobierno vasco en la upv lo que es realmente preocupante es que nos tengan que decir no podremos prestar a la sociedad vasca el servicio que esta demanda de upv ehu

en un contexto universitario cada vez más exigente hor dago larritasuna hor dago esaten denean

larrion andrea como le decía en mi primera intervención este país tiene su propio sistema de financiación

que se basa en el acuerdo y la determinación de objetivos y prioridades concretas en un escenario temporal concreto

pero en lo que se refiere a la parte competitiva porque la financiación de la universidad no solamente es una financiación estable fija no tiene también su parte competitiva en lo que se refiere a la parte competitiva desde la viceconsejería de universidades e investigación

en programas competitivos vinculados a la excelencia en investigación estos programas están orientados en gran medida hacia la contratación de personal predoctoral postdoctoral

asimismo dentro de esta cantidad se integra aquella destinada a financiar a los centros de excelencia de la red berc una inversión que asciende a once millónes de euros cada año

así pues la inversión en programas competitivos una vez sustraídas estas cantidades se eleva a veinte millónes de euros al año por cierto

achucarro y polymat así como el resto de todos los centros de excelencia be ce tres bcbl todos todos tienen una vinculación directa con la upv ehu

referentes siendo mucho que ellos firman sus artículos y piden sus proyectos con la afiliación de la upv

forman el ecosistema de investigación de excelencia universitario vasco que es un ecosistema tremendamente rico en personas proyectos y resultados y que cuentan con una financiación que asciende a setenta millónes de euros

pues bien como sabrá en todos estos programas del departamento de educación la mayor beneficiaria de las ayudas directamente o a través de los centro berc y del programa ikerbasque es la propia universidad del país vasco

además a esta inversión hay que sumar la que realizan otros departamentos como el departamento de desarrollo económico y de infraestructuras que tiene programas competitivos a los que pueden presentarse los agentes de la red vasca de ciencia y tecnología e innovación de la que forma parte también la upv ehu

en armonía con los contenidos de la ley catorce barra dos mil once de ciencia tecnología e innovación así como dentro de la autonomía universitaria se le trasladó en una reunión bilateral

y posteriormente por escrito la solicitud de la modificación correspondiente de le ley orgánica seis barra dos mil uno de veintiuno de diciembre de universidades

una resolución en la que se indicaba una prórroga durante un año en el nombramiento de los directores y directoras de los centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes del departamento de educación que finaliza su mandato el treinta de junio del dos mil diecisiete una resolución que afecta a un total de ciento tres directores y directoras de centros públicos de enseñanza no universitaria de los cuales cincuenta y uno han presentado por iniciativa propia solicitud de renovación de su mandato para un segundo periodo hasta

y que por tanto no tienen interés en seguir formando parte de la dirección del centro cuántos de ellos han renunciado formalmente se ha preguntado la consejera por qué estos cincuenta y dos directores y directoras no han pedido su renovación cómo se van a seleccionar las direcciones de estos cincuenta y dos centros cuando aun la consejera no ha publicado la convocatoria y normativa necesaria para que hubiera habido concurso en las direcciones públicas

conscientes de la complejidad que supone las direcciones de los centros y conscientes de la necesidad de urgencia que existe en la actualidad por cuidar el liderazgo escolar de los centros educativos y consolidar direcciones estables para los centros públicos desde elkarrekin podemos pedimos a la consejera de educación cristina uriarte que responda a la siguiente pregunta

en el decreto veintidós barra dos mil nueve de tres de febrero lo que hubiera permitido sacar a tiempo la orden de convocatoria para un nuevo proceso selectivo de direcciones con proyecto habida cuenta que desde el dos mil trece se conoce la necesidad de introducir estos cambios mila esker

hitza esto no acaba aquí

en respuesta a un recurso de alza presentado por una de las personas afectadas por la resolución veintiuno de febrero del dos mil diecisiete de la viceconsejera de educación da la razón a la demandante

esta orden deja sin base legal todo lo previsto sobre la prórroga de las direcciones de los centros públicos diciendo que no se ajusta a derecho

una resolución que lo que hace es más bien intentar tapar nuevamente la mala gestión del departamento de educación en la resolución veintiuno de febrero se indica que la lomce ha introducido cambios en la normativa básica reguladora

artículos de nuestro decreto que el departamento de educación tramita en la actualidad y la cuestión es ahora lo está tramitando

ha tenido cuatro años el departamento para modificar el decreto

hasta cuándo no tenemos autonomía suficiente para poder modificar nuestro decreto de manera que las direcciones de los centros vascos

en definitiva otro caso más de mala gestión y de falta de respeto con las direcciones de los centros de la escuela pública este es el sistema educativo vasco de excelencia hacia el que caminamos cuidemos al personal educativo pero cuidémoslo de verdad sin duda alguna
otro ejemplo más de cuidado y respeto que este gobierno tiene hacia la escuela pública vasca mila esker eskerrik asko macazaga anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

señora macazaga es muy sorprendente que sea el grupo elkarrekin podemos quien plantee esta pregunta

de acuerdo en minimizar los efectos derivados de la aprobación en el parlamento español de la lomce

en la selección de directores y directoras de centros ustedes nos preguntan por qué no hemos introducido las modificaciones en nuestro decreto antes

y son dos objetivos que nos deben guiar y no debemos perder de vista también me van a permitir que recuerde que en el acuerdo de este parlamento se insta

pues bien en lo que refiere a que este parlamento vasco instará al gobierno de españa a que solicitara el ingreso como socio fundador

tengo que decir que no me corresponde responder sobre el cumplimiento del estado de esa solicitud tendría que ser el propio gobierno de españa quien explicara los pasos que haya podido dar para el cumplimiento de lo acordado sin embargo sí puedo informarle que este gobierno vasco acordó con el gobierno de españa remitir una carta conjunta que fue remitida al council del ess eric en mayo del dos mil diecisiete en

cumpliendo los objetivos que euskadi se ha marcado y a los que me he referido antes horrez gain gehitu nahi nuke jaurlaritza honek azpimarra berezia

es evidente que hay algunas cosas que se piden a otras administraciones pero usted

y es que este es un tema que ya no nos fiamos realmente no nos fiamos de la voluntad de ninguna de las partes porque se está gestionando de una forma pésima en la sede de la fuente europea hace un dafo tienen hecho un dafo un análisis de los riesgos del proyecto de las oportunidades

el segundo riesgo es la inestabilidad que genera el estado español en el proyecto porque el estado español todavía

a dar suministros que son esenciales para un proyecto europeo es que estamos haciendo el ridículo

si prefiere por no ser capaces de dar una estabilidad a este proyecto y es que

si tiene que seguir adelante o no ya con lo que se ha avanzado con los compromisos que se han adquirido

es cumplir su parte y decirnos si el gobierno está cumpliendo la suya

se ha convocado el consejo rector con qué orden del día de la convocado bueno pues si me está asintiendo ahora pues venga a contestarme porque precisamente

porque se necesita un calendario de financiación y se necesita ya en estos momentos la dirección

económicas fundamentales una para cumplir con las licitaciones

los despidos posibles a día treinta y uno de diciembre porque es el momento en el que se le agota el dinero esos son los cálculos que están haciendo en estos momentos

en este proyecto que como comentaba con ellos en bromas tienen que estar preocupados por los neutrones y no por los millónes y ustedes han hecho que esté todo el mundo desde los trabajadores hasta

puntero por tanto yo les pido por favor que sean serios porque aquí nadie sabe nada y es evidente que este acuerdo

de las peticiones que requieren un espacio temporal más amplio pero la primera ya ha dado plazo de un mes y ese plazo de un mes no se está cumpliendo sean ustedes serios porque esto estamos dando el espectáculo y es que se les nota además

es que les falta cariño hacia este proyecto pero es que se les nota a la legua porque están sumiéndolo en una situación que realmente no es de recibo

que aprueben el calendario de financiación y que terminen con el culebrón en el que han convertido lo que estaba llamado a ser un proyecto ejemplar en el ámbito de la investigación porque como decía anteriormente este proceso no puede tener marcha atrás porque dejaría en el aire no solo

del proyecto europeo por tanto les digo que sean serios que cumplan su responsabilidad que no se escuden en lo que hagan o dejen de hacer otras administraciones sino que la parte correspondiente al gobierno vasco aporten y pongan sobre la mesa

para responder más concretamente a su pregunta puedo decir que entiendo que la carta a la que me he referido y que fue remitida al council tras un acuerdo con el gobierno español abre la puerta a que españa solicite el ingreso como socio fundador en el plazo establecido por el ess eric que concluye el dieciocho de abril en dos mil dieciocho perdón

por otra parte como sabrá el gobierno español está en proceso de aprobación definitiva de sus presupuestos por lo tanto lo que la segunda parte del acuerdo del este parlamento está condicionada a dicha aprobación y también la primera

que deberá ser reintegrada además dicho endeudamiento deberá ser acordado y aprobado en el consejo rector de ess bilbao pero cuando estén los presupuestos acto que no puede llevarse a cabo por eso porque no están los presupuestos del estado no están aprobados quiero añadir que este gobierno a través

en que se cumplan los objetivos fundamentales tanto en lo que se refiere a su papel como medio para realizar la aportación vasca

como en el desarrollo de ciencia y tecnología en el campo de la aceleración de partículas en euskadi que esto es prioritario en este sentido le informo de que se han mantenido diversas reuniones con la dirección de ess bilbao con representantes del ministerio de economía industria y competitividad del gobierno español y con diversos agentes además hemos participado en el council del ess eric celebrado el uno y dos de junio

con el fin de avanzar en la consecución de los objetivos citados siempre defendiendo los intereses de euskadi que es el principio que guía este gobierno vasco y que entiende parte fundamental del acuerdo de este parlamento vasco

o que deben tener carácter institucional transversal y obligatorio eskerrik asko arana andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

entre las conclusiones del informe se destaca que existe una brecha de género importante en la escuela vasca es un informe completo han participado practicante la totalidad de todos los centros educativos

en el informe de dos mil dieciséis sobre maltrato entre iguales se destaca que un doce coma dos por ciento del alumnado de primaria dice sentirse excluido por ser chica en la eso el porcentaje es aún más alto la discriminación lo sufre un alumnado

y un once coma nueve lo sufre por rumores sobre su orientación sexual señora uriarte el informe sobre igualdad de género en educación primaria y de eso

solo un cuarenta y seis por ciento de los planes de primaria abordan la detención y prevención de la violencia de género

un cincuenta y cinco por ciento aborda estos temas solo en actividades muy puntuales aunque reconocemos avances los datos revelan que quedan muchísimo por hacer para la transformación

en el segundo plan director se continúa promoviendo la transformación a la escuela coeducativa

para cito textualmente solicitar la realización de proyectos de actuación que les permita abordar la coeducación y la prevención de la violencia de género de esta manera

el compromiso o la sensibilidad de las direcciones de los centros el impulso de proyectos coeducativos y de prevención

la convocatoria a centros concertados de dos mil catorce participaron treinta y cinco centros en dos mil quince treinta y dos en dos mil dieciséis diecinueve centros este año creo que no hay convocatoria en la convocatoria de dos mil quince a centros públicos participaron cuarenta y ocho centros

cree usted realmente que estos datos son buenos estos datos nos afirman que el interés por participar de estas convocatorias y digo interés desciende de forma progresiva

porque no puede quedar a voluntad de los centros educativos promover la coeducación y la prevención de violencia de género

porque además por principio las políticas que promueven derechos humanos no pueden quedar a voluntad de las personas individuales no pueden quedar a voluntad de las direcciones de los centros porque entonces no se realiza y de hecho como muestra un botón los informes que le acabo

el mensaje que el departamento da con esta convocatoria es señores de los centros educativos la coeducación y la prevención de la violencia de género son opcionales ustedes decidan las políticas de igualdad las cuales tienen el cometido de garantizar una sociedad igualitaria y justa para mujeres y hombres deben ser transversales e institucionales pero además

porque los datos demuestran que esta convocatoria no obtiene la respuesta deseada y no la modifican continúan con la misma opción que

cuenten con nosotras vamos a apoyar y a acompañarles todos los procesos

pero ojo seremos exigentes siempre que sean planteadas como accesorias secundarias u opcionales

y con un abordaje más integral las actuaciones inicialmente identificadas a llevar a cabo

actuaciones dirigidas al alumnado estereotipos interaccional utilización de espacios prevención de violencia de género educación afectivo sexual orientación académica

formación de todo el claustro formación y participación de familiares formación y participación de agentes socio comunitarios

y tienen que tener el respaldo institucional estamos hablando de políticas transversales que van más allá de la escuela

pero la política de la imposición no debiera ser la vía de conseguir que realmente alcancemos una sociedad igualitaria eskerrik asko uriarte

señora consejera hoy queremos hablarle de la universidad del país vasco de la upv y en relación con los ranking

un ranking importante que es el que elaboran conjuntamente la fundación bbva junto con instituto valenciano de investigaciones económicas el llamado u ranking para el año dos mil diecisiete

certifica que las cinco mejores universidades españolas

son públicas pero ninguna de ellas es la universidad del país vasco concretamente este ranking general de u ranking dos mil diecisiete clasifica once escalones en la que

en el sexto escalón también según este ranking

el que mejor sistema universitario tiene es cataluña seguido de cantabria comunidad valenciana islas baleares y

en cuanto al ranking de docencia tampoco nos deja bien porque de nueve escalones la upv se sitúa en el escalón quinto

periódico el mundo coloca a la upv en la posición número catorce

nos coloca entre los puestos cuatrocientos uno y quinientos

dos mil doce la upv ocupaba una posición

estábamos entre trescientos uno y el cuatrocientos

y aceptación la pregunta es señora consejera por qué

de euskadi no remonte el vuelo y no se sitúe entre las mejores no ya internacionales que podía ser un objetivo que quizás para usted demasiado ambicioso pero sí de españa qué opinión le merece esta situación aún más importante qué va a hacer usted como consejera como responsable política qué va a hacer su gobierno para intentar revertir esta posición de la upv mediocre

que existe una amplia diversidad de rankings indicadores dimensiones etcétera

quienes deben dedicar mucho tiempo y recursos a aportar datos en múltiples formatos a las organizaciones que los tutelan y muchas veces no participan en todos

variado al igual que los criterios y variables seleccionadas para construirlos así

algunos de ellos promovidos por instituciones privadas como la fundación bbva y el instituto que acabo de citar y también hay otros como el ranking primero ugr de universidades españolas o el ranking cyd de la fundación conocimiento y desarrollo

o el observatoria de la actividad investigadora de la universidad española como digo entre otros muchos del ámbito estatal más allá de estos rankings de ámbito estatal existen otros rankings de ámbito internacional que cubren un espectro mucho más amplio y quizá relevante y que gozan de un mayor prestigio que aquellos de ámbito regional o estatal

higher education el más reciente cwts leiden ranking

que es el de mayor reconocimiento internacional la universidad pública vasca goza de una buena posición en estos rankings internacionales de hecho usted lo ha dicho la upv ehu se encuentra entre las quinientos mejores universidades del mundo según el ranking de shanghai

además destaca en el ámbito de las matemáticas encontrándose entre las ciento cincuenta primeras universidades así como en el área de las ingenierías encontrándose entre las doscientos primeras a nivel mundial

universidades mejores del mundo de menos de cincuenta años según el times higher education ranking

supone una cualificación añadida ya que en él la educación y la innovación tienen un peso apreciable finalmente university ranking y en el cwts leiden ranking nuestra universidad pública destaca

la universidad tenga una posición lo más relevante posible tengo un interés personal señora consejera soy licenciado mi título está otorgado por la universidad del país vasco con lo cual quiero que mi universidad porque esto me vendrá bien al currículum esté en los

todo estupendamente bien sobre todo ustedes que este gobierno pues no tiene ningún tipo de fallo y que

aunque lo primero puede ser discutible es que la universidad pública de euskadi no está considerada como una referencia en los rankings nacionales y es verdad que a lo mejor usted lo ha despachado de una manera muy rápida y es aquellos datos que no le convencen pues oiga

relativa pero los docentes los alumnos la comunidad educativa en general no solo la vasca sino el conjunto de la española y lo que nos dicen también los rankings importantes como es

es que hay mucho campo de mejora y la pregunta razonable señora consejera es qué piensa hacer su gobierno para que volvamos por lo menos a estar en la posición del año dos mil doce del ranking de shanghai qué vamos a hacer qué va a hacer usted

la upv aparezca en los puestos primeros qué vamos a hacer

me parece que usted no quiere entender porque no le interesa simplemente el hecho de que haya distintos rankings tienen distintos criterios distintas variables

por lo tanto no se puede medir a todos por el mismo nivel o sea entonces cada uno toma sus referencias y este es el caso de la universidad del país vasco que tiene sus referencias puestas

rankings nacionales eso cuestión de la autonomía universitaria

que es evaluado por unibasq que es lo que realmente a nosotros nos interesa para seguir realmente que la universidad va cumpliendo con los objetivos que se va planteando

también nos fijamos en otros datos que nos trasladan a otros rankings de prestigio internacional como lo he mencionado anteriormente en los que la upv ehu como le he dicho y también el resto de universidades del sistema universitario vasco está consiguiendo un buen posicionamiento a nivel internacional

sobre todo en los que son referentes y más si lo son internacionalmente no utilicemos la variedad de rankings de forma interesada y poco constructiva

gracias señora presidenta buenas tardes ya a todos señora consejera tras la modificación de la instrucción veintiuno sobre la tenencia y uso de armas de fuego de la ertzaintza

todas las autorizaciones de portar el arma reglamentaria fuera de servicio en la mesa de valoración de amenaza terrorista del ministerio del interior de finales de mayo pasado se decidió mantener el nivel cuatro de alerta terrorista

y en estas circunstancias de riesgo alto de atentado terrorista los responsables políticos y policiales de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y otras policías

aconsejan portar el armar reglamentaria fuera de servicio en todo momento sin embargo en euskadi se modifica la instrucción veintiuno que regula las condiciones como digo en la que los ertzainas pueden portar este armar y a partir de ahora solo lo podrán hacer en supuestos excepcionales

cuando se ha alertado de una campaña contra las fuerzas de seguridad y en especial contra las mujeres policías no es comprensible que se mermen

a acciones terroristas en salvaguarda de la propia integridad de los agentes y de los ciudadanos y ciudadanas vascas por ello señora consejera

eskerrik asko mahaiburu andrea en primer lugar señora llanos usted sabe bien que en la ertzaintza portan armas todos y todas las ertzainas que

prestan y que tienen asignadas pero evidentemente el hecho de portar un arma reglamentaria tiene que conllevar su correspondiente regulación y la

aspectos establece como criterio general que una vez concluida la jornada laboral las armas cortas reglamentarias deben depositarse en los locales

la instrucción establece que esta obligación genérica es plenamente compatible con la obligación que impone la propia ley de policía del país vasco de intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar incluso fuera de servicio en defensa de la ley

se considera que estas intervenciones que pueden producirse fuera de servicio son de carácter ocasional e imprevisible y que por su propia naturaleza no se configuran con las mismas cuotas de intensidad eficacia técnico policial

el servicio la instrucción también contempla que excepcionalmente se podrá poseer una segunda arma también reglamentaria y esa excepcionalidad la determina

a criterios de eficacia operativa a partir de ahí pues mire asociar lo que supone una regulación administrativa de los permisos para portar armas

tarea que teníamos pendiente desde hace algún tiempo con los riesgos

simple y llanamente que está injustificado y que es una alarma innecesaria eskerrik asko beltrán de heredia andrea llanos andrea zurea da hitza

es obligado dotar de medidas de salvaguarda de la integridad física de nuestros agentes

usted dice como bien ha dicho que el artículo treinta y tres de la ley de policía vasca les obliga

que actúe un agente qué hace con el terrorista si se lo encuentra que está atacando y no puede llevar el arma porque no se le ha autorizado le estoy diciendo hay otras policías

que están recomendando a los agentes a que en todo momento

les están recomendando que lleven el arma

salvaguardar su propia seguridad y de esa manera también la de los ciudadanos mire durante mucho tiempo los agentes han dicho que no se ha puesto por parte de su departamento los medios materiales suficientes ante esta nueva amenaza principalmente en lo que se refiera a armamento uniformidad y vehículos

de portar armas otras policías europeas están siendo cuestionadas precisamente por este asunto precisamente por la prohibición de portar armas y están cambiando de opinión el sindicato erne en alguna ocasión también ha denunciado y

también lo ha denunciado y usted me habla aquí de alarma mire es que no me sorprende cuando yo puse de manifiesto en esta cámara que no se estaban adoptando las medidas suficientes ante una amenaza

usted me dijo que estaba causando alarma cuando el sindicato erne lo puso sobre la mesa usted dijo que se estaba causando alarma

era incorrecto se les acusó de causar alarma

pero qué casualidad lo que ellos proponían entonces es lo que ahora ha hecho el ayuntamiento entonces el ayuntamiento ahora está causando alarma señora consejera

es cuestión de que a lo mejor hay un sucedido desgraciado y que todos debiéramos de evitar y entonces se cambia esa instrucción y yo no quiero tener que venir aquí un día a cuestionarle que haya ocurrido una desgracia

a esta instrucción esa desgracia no se haya podido evitar yo aquí lo que le vengo precisamente es a solicitar que tome esas medidas porque es su obligación porque después no vale nada lamentarse que las tome antes
para salvaguardar la integridad como le digo de los agentes y la de los ciudadanos que tienen que defender eskerrik asko

beltrán de heredia andrea zurea da hitza eskerrik asko espero yo también que no tenga que venir a cuestionarme por esa
cuestión que usted ha planteado ni tampoco porque se ha usado el arma reglamentaria fuera de servicio de una manera no adecuada directa de eta y el hostigamiento de su entorno más radical las medidas de seguridad y de protección personal se intensificaron

a que a su vez se estableciera un procedimiento para la utilización de portar arma reglamentaria fuera de servicio

nueva instrucción es una actualización administrativa de la situación esto es volver a regularizar los permisos el arma reglamentaria fuera de servicio simple y llanamente eso y para eso se ha establecido un plazo de tres meses para actualizar los permisos para portar arma reglamentaria fuera de servicio yo creo que salvando las distancias es fácil entender que lo mismo que

permisos el dni el permiso de conducir las licencias de caza

renovar y regularizar la situación cada vez que se nos requiere que es lo que tenemos que hacer en este caso los y las ertzainas que disponen de arma particular

hacer esas renovaciones en los plazos que les corresponden pues lo mismo ocurre en el caso del porte del arma reglamentaria fuera de servicio

al comienzo de mi intervención en la ertzaintza portan armas todos y todas las ertzainas que tienen que hacerlo en relación con las funciones de seguridad que tienen

también también pero solamente en función de las circunstancias que se den y que

señora consejera el pasado cuatro de junio se celebró en las instalaciones de la ertzaintza de erandio el acto anual de entrega de condecoraciones y de homenaje

policial y de homenaje a los fallecidos en acto de servicio este acto fue presidido por urkullu que estaba acompañado por los máximos responsables de su departamento del departamento de seguridad y de la ertzaintza con usted a la cabeza representantes de la secretaría de paz y convivencia de la asociación de ertzainas y familiares de víctimas del terrorismo

familiares y amigos de las personas homenajeadas sin embargo los representantes de los vascos y de las vascas es decir nosotros los parlamentarios no fuimos invitados a dicho acto

de la ciudadanía no sean invitados a participar en un acto

al servicio de los derechos de la defensa de los derechos y libertades de toda la ciudadanía por ello queremos preguntarle señora consejera cuál es la razón que nosotros los parlamentarios que somos los máximos representantes de los vascos y de las vascas no fuimos invitados a participar

en la anterior legislatura ya en dos mil trece en relación con esta celebración adoptamos cuatro decisiones cuatro decisiones compartidas con adepyr asociación de ertzainas pensionistas y jubilados y aserfavite asociación de

la primera decisión fue el hacer coincidir el homenaje

fallecidas en acto de servicio con la entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial condecoraciones y felicitaciones que se conceden anualmente en aplicación del decreto que

de condecoraciones y felicitaciones honorificas de la ertzaintza decreto que es

adoptamos una segunda decisión que fue instituir la fecha de su celebración y acordamos que el acto coincidía siempre con el primer domingo de junio una tercera decisión fue la de solicitar cada año que este acto fuera presidido por el lehendakari como así viene siendo y también nos pareció importante darle un carácter territorial rotativo acorde al despliegue de la ertzaintza y la posibilidad física de

de la organización primer año como lo hicimos en la academia vasca de policía y emergencias en arkaute el segundo año fue en la central de erandio el tercero en dos mil quince en

desde el comienzo ha sido un acto centrado fundamentalmente en los familiares de las víctimas y en el personal condecorado y sus familias y abierto evidentemente a todos y a todas las

por nuestra parte no ha cambiado nada desde el primer momento que como he dicho con la asociación de pensionistas y jubilados y la asociación de familiares y víctimas de la ertzaintza adoptamos estos acuerdos seguimos

este acto cada año con los mismos criterios desde luego en ningún momento hemos contemplado que hubiera otro tipo de representación institucional ajena a las

o condecoradas e insisto en ningún caso se ha hecho y se ha organizado este acto con carácter excluyente eskerrik asko eskerrik asko

señora consejera usted lo ha dicho en otras ocasiones y yo lo comparto si hay una institución en euskadi que está bien valorada

es y siempre ha sido una policía cercana una policía comprometida con los derechos y libertades una policía que ha puesto en riesgo y en muchas ocasiones ha dado la vida por la ciudadanía vasca

por esta y como le digo los representantes de la ciudadanía vasca en esta cámara debiéramos de poder participar en ese homenaje no sé si lo que usted me está queriendo decir es que son

de ertzainas asesinados por eta o los familiares de los condecorados los que no quieren que

estemos en ese homenaje en el que otras veces sí hemos estado yo he asistido a ese tipo de homenajes cuando el consejero entonces de interior era el señor ares

porque como le decía toda la ciudadanía vasca debemos reconocimiento y homenaje a quien vela por los derechos y libertades

que todavía le debe más a la ertzaintza ese es el grupo popular

hayamos podido ejercer nuestra labor política a pesar de la amenaza terrorista y queremos participar en ese reconocimiento en el reconocimiento de aquellos que fueron asesinados

pudiéramos conservar la vida y pudiéramos conservar la posibilidad de hacer política y nuestra seguridad y también a todos aquellos que sin haber sido asesinados sí en la salvaguarda de los derechos y libertades ha dado su vida y aquellos

las han homenajeado yo creo que usted confunde una cosa dice que

ustedes el gobierno vasco son los que debieran invitarnos a todos los representantes de la ciudadanía a participar pero ustedes no lo hacen y no lo hacen por una cuestión

que no es la policía de todos los grupos políticos y por eso precisamente no quieren participar a ningún grupo político en ese homenaje y yo creo que precisamente

que es la garante de los derechos y libertades como digo de toda la ciudadanía

debiera de invitar a que los representantes de la ciudadanía que somos los grupos parlamentarios

en ese acto y yo le solicito que en futuras ocasiones nos invite porque como digo sino estará mostrando una actitud sectorial y excluyente nada más y muchas gracias

señora llanos le he explicado los criterios básicos que adaptamos en la celebración de este homenaje el resto las argumentaciones que usted ha planteado aquí además de

a las que ustedes están invitados son criterios sobre todo le he dicho antes centrados en el protagonismo y en el reconocimiento de las

y condecoración criterios que son ampliados asimismo a los familiares y también a las instituciones representadas por las personas condecorados sobre todo por la propia ertzaintza e insisto jamás nos hemos planteado en la celebración del acto desde criterios excluyentes para nadie y muchísimo menos esta institución que es el parlamento vasco de todas maneras cinco años llevamos celebrándolo de la misma manera creo que de verdad hubiera sido mucho más eficaz

pregunta en un pleno de control después de cinco años de celebrar

que hubiera bastado con plantear su interés por
a este acto cinco años después eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia